señores señoras consejeros señorías buenos días a todos la señora ubera nos ha hecho un diagnóstico sobre la situación en la que se encuentra en estos momentos el empleo público vasco y nos ha propuesto una herramienta para corregir los problemas que a su entender

los trabajadores que desempeñan su vida profesional en el sector público de la comunidad autónoma vasca

la señora ubera la semana pasada bueno no hace ni siquiera una semana

nos hablaba de cuando le preguntaban por la situación del empleo en la comunidad autónoma vasca y él decía que iban a seguir creando puestos de trabajo y empleo de calidad

yo entiendo que eso lo dijo nosotros se refería entiendo a todo el consejo de gobierno usted es el mayor empleador de euskadi señor urkullu usted dirige la mayor empresa pública

y de usted y de sus decisiones dependen cientos de miles de personas

en cuanto a responsabilidades sobre trabajadores o número de trabajadores y usted nos dijo que quería seguir creando

que yo sepa en términos absolutos el empleo que había público

a principios de esta legislatura es el mismo prácticamente que el que hay ahora es decir no se ha generado empleo nuevo

dentro de las administraciones públicas y entran nuevos trabajadores y si no está creando empleo menos está creando empleo de calidad señor urkullu porque cuando

una de las primeras cuestiones que se analizan siempre es la temporalidad en el empleo si se habla de precariedad en el empleo cuando un puesto de trabajo es temporal cuando un puesto de trabajo no es fijo

precario y que como tal hay que tender a convertirlos en puestos de trabajo indefinidos para

una carrera profesional y un proyecto de vida personal en función o en torno a ese puesto de trabajo de hecho en el momento en que los jóvenes tienden

en la empresa privada o en el sector público una de las fundamentales causas por las que tienden a ir al sector público es por la estabilidad en el empleo

que eligen ese sector por vocación porque esos puestos de trabajo a los que ellos han querido llegar siempre pues solamente se dan dentro de la función pública veamos ahí el caso

en el sector privado esos puestos de trabajo no existen si uno quiere ser dedicarse a los temas sociosanitarios pues de una gran manera o una manera muy importante tendrá que dedicarse al sector público porque

el sector privado es mucho menor en cuanto a la oferta de puestos de trabajo pero la gran mayoría de los trabajadores públicos eligen ese sector no por vocación sino por la estabilidad y la estabilidad señor urkullu dentro del sector público que usted dirige

lejos de mejorar ha empeorado como bien ha dado los datos la señora ubera hace unos minutos entre tres y cuatro de cada diez de los trabajadores públicos no son fijos si la gente accede a la función pública tratando de conseguir

lo que consigue es todo lo contrario un puesto de trabajo inestable que queda en el aire y que en cualquier momento lo puede perder pues consigue que la función pública no sea atractiva

ni crea puestos de trabajo ni son de calidad en el sector público esa es mi opinión

ese es el diagnóstico que nos ha hecho la señora ubera y posteriormente nos ha propuesto una herramienta una herramienta

para acabar con la interinidad que tiene ahora mismo el sector público

siempre he pensado me creía aquello de que quien quiere optar a un puesto en la función pública tiene que hacerlo de acuerdo con los principios de igualdad mérito y capacidad y yo creo que el sistema que usted nos propone

no van a competir en iguales condiciones aquellos que no han trabajado nunca la función pública con aquellos que llevan unos años no por su culpa evidentemente sino por la mala gestión

a esa situación en la que tienen que competir quienes tienen una experiencia larga y dilatada en un puesto determinado

esos principios de igualdad mérito y capacidad no entraron allí en esas condiciones y ahora si van a estar privilegiados frente a los que

se rompen y por lo tanto nos estamos cargando el sistema de acceso a la función pública en los términos que la legislación básica

hace mucho tiempo que había que traer a esta cámara o había que tramitar en esta cámara la ley del sector

en la anterior legislatura que se trajo tarde y mal cuando ya todos sabíamos que no iba a dar tiempo a tramitarla pero el gobierno dijo que la culpa era del parlamento

de la legislatura y este año han vuelto a hacer exactamente lo mismo la han traído antes antes de que finalice la legislatura

que si esa ley no se está tramitando es por culpa del parlamento que el gobierno ya ha cumplido elaborando ese proyecto de ley y presentándolo a la cámara

que no es cierto porque yo no creo que sea culpa de los parlamentarios ni de la comisión que no se está tramitando esa norma una norma que es cierto que usted no ha presentado porque nadie le ha llamado para presentar esa norma el vicio viene de atrás

señor erkoreka porque esa norma usted sabe perfectamente que no va a salir adelante no cuenta con los apoyos de los trabajadores y así nos lo han manifestado todos los representantes de los trabajadores todos los sindicatos asociaciones profesionales que están dentro y fuera

están en contra del contenido de ese proyecto de ley que usted ha traído a la cámara luego con eso es muy difícil que ese proyecto de ley salga adelante desconozco la situación del resto de los grupos porque

a nosotros nadie del gobierno nos ha llamado para negociar ese proyecto de ley para sacarlo adelante

en los que poder enmendar determinados asuntos y poder sacarlo adelante traer

y usted sabe perfectamente que leyes que se han presentado con posterioridad a la de empleo público de la comunidad autónoma vasca se están tramitando incluso conoce perfectamente que ha habido leyes que con un par de reuniones de la ponencia

luego venir aquí y decirnos que si no se está tramitando esa ley es por culpa del parlamento

un poquito de desvergüenza si me lo permite señor erkoreka porque usted está paralizando precisamente que esto no salga adelante porque esa comisión está tramitando proyectos de ley que han llegado más tarde y usted no quiere venir a presentar ese proyecto de ley

de los representantes de los directamente afectados que son los trabajadores de la función pública y de ahí el problema que vamos a trasladar a la siguiente legislatura que es que la

creciendo eso no quiere decir que vayamos a apoyar la solución que nos ha propuesto eh bildu hoy porque repito entendemos que no tienen las garantías suficientes

que de la mano de la ley de cuerpos y escalas igual metemos de sopetón también la tramitación necesaria para

esa ley tendría que ir exactamente a la misma comisión que usted dice que está atascada y en la que no sale nada y se supone que va a llegar después de la que ya nos presentó en febrero de este año por qué confía usted en que salga adelante una ley que va a la misma comisión que es culpa de los parlamentarios que no se esté tramitando y esta que llega más tarde

que van a traer al gobierno dentro del mismo año porque sinceramente creo señor erkoreka en tema de función pública nos tomaron el pelo la legislatura pasada y nos están tomando el pelo

realmente yo no tengo claro y se lo digo muy en serio que su iniciativa de hoy tenga las suficientes garantías jurídicas

aplicarla podría llevarnos a tener una situación mucho peor de la que estamos viviendo que ya de por sí es bastante mala usted sabe que si hay un sector que suele terminar defendiendo sus intereses en los tribunales es precisamente el sector la función pública y la historia nos dice la historia reciente y la historia reciente dentro de la comunidad nos dice claramente que cuando se han hecho mal las cosas las soluciones han sido mucho más dolorosas que si se hubieran hecho bien desde un principio ope recurridas ope que llegan a los tribunales y son anuladas que suponen un cambio fundamental dentro de sectores de la administración y un desbarajuste para todas las personas que habían visto con buena intención sus problemas solventados presentándose a los exámenes y obteniendo una plaza que posteriormente

ese derecho al acceso a la función pública y los derechos adquiridos como trabajador y ahí vienen todos los problemas y por eso le digo señora ubera que yo no considero que la solución que nos propone usted a este problema tenga las suficientes garantías jurídicas creo que es un sistema

como para que sea el gobierno el que tiene que plantear una iniciativa de verdad jurídicamente bien

como para que la puesta en marcha no acabe destrozando la vida de muchos de los trabajadores de la función pública vasca y eso si es que consideramos que el gobierno

porque ni esta legislatura parece que haya hecho nada por hacerlo ni la anterior tampoco la anterior tampoco gracias señor lehendakari pues eso que llevamos tres legislaturas

los socios del gobierno actual que no ponen fin a este problema de la interinidad y acaba uno por preguntarse si es que

que igual esa situación de interinidad y de precariedad en el empleo público es lo que interesan a los sucesivos gobiernos de esta comunidad para de alguna
manera solventar los problemas que tiene en otros sitios muchas gracias eskerrik asko

buenos días a todos egun on guztioi no hemos apoyado la toma en consideración de la proposición de ley que ha presentado eh bildu relativa a la estabilidad del empleo público fundamentalmente porque este parlamento ya tiene en su poder un proyecto de ley remitido por el gobierno precisamente sobre eso sobre el empleo público en concreto es la ley de empleo público que ya contempla esta regulación de procesos de consolidación

ese mal endémico de las administraciones que es la alta tasa de temporalidad cosa que comparten tanto el preámbulo de la proposición de ley como la del proyecto de ley presentado a esta cámara este proyecto de ley que remitió el gobierno tal y como se recoge en su exposición de motivos se entronca

que mantiene elementos del modelo vigente pero que propone cambios sustantivos

o el sistema retributivo es un proyecto que también posibilitará y lo sabe la señora ubera activar elementos más innovadores todo ello con un objetivo claro que parecemos compartir en esta tribuna que es la mejora de la calidad del empleo público vasco no se persigue un empleo público pues con un alto grado de profesionalización

responsable con la gestión de sus resultados un proyecto de ley que desde luego no es comparable desde nuestra perspectiva con la proposición presentada por eh bildu

que el proyecto de ley de empleo público no sean eficaces para la consolidación del empleo público porque tal y como se recoge también en el criterio del gobierno

ocupa tres páginas eh bildu lo que recoge en su proposición es una copia mutilada sin garantías y técnicamente defectuosa y lo saben de las disposiciones

que creemos como objetivo que el objetivo de la proposición de ley es construir un buen sistema sólido un modelo cercano y eficaz

en cuatro artículos y cinco disposiciones lo que estamos haciendo es simplemente

es una proposición que no tiene copyright de los presentadores en la que se han dedicado simplemente a copiar un párrafo sí y cuatro párrafos no del texto ya presentado por el gobierno en una medida concreta

no va a validar como tampoco hemos respaldado esta curiosa forma de enmendar un proyecto de ley que está en este momento en trámite en este

de los instrumentos que ya están incluidos en el proyecto de ley podrán presentar sus propuestas de mejora entiendan necesarias desde la perspectiva que ustedes tienen de cómo crear ese modelo sólido cercano y eficaz que pretenden en estos cuatro artículos

y me explico que se pretenda tramitar mediante proposición de ley una parte

como una auténtica enmienda anticipada la verdad no nos parece un buen procedimiento ni tan siquiera una buena opción yo podría entrar en otros detalles de la propuesta

algunos hemos tenido la oportunidad de leerlo con detenimiento seguro que aquellos que bajamos a intervenir a esta tribuna lo hemos hecho y cualquiera de sus señorías pues pueden hacerlo si quieren verdad consultando el expediente

voy a finalizar mi intervención manifestando que los socialistas

que la administración vasca no puede permitirse perder el conocimiento del capital humano de tantos funcionarios que son interinos por circunstancias ajenas a su voluntad personas que han desarrollado sus funciones con profesionalidad y dedicación aun a pesar de la larga

y por ello creemos que si los grupos realmente lo que perseguimos no es un titular ni rellenar

puestos de trabajo estabilizar la situación del empleo público garantizar el buen hacer de los funcionarios lo que deberíamos hacer nosotros los parlamentarios es desarrollar nuestro buen hacer también

teniendo voluntad de avance en la tramitación y aprobación del proyecto de ley de empleo público remitido a veces creo que los retos nos asustan se hablaba de abrir puertas al diálogo y al acuerdo pues es a los grupos parlamentarios no al gobierno al que le toca en este momento hacerlo están ustedes por esta labor o enredaremos y divagaremos como lo estamos haciendo en otros proyectos de ley yo espero que este no sea otro caso más de los que estamos viendo últimamente

egun on legebiltzarkideok voy a voy a ceñirme

utilizar un turno de explicación de voto para entrar a debatir directamente con el grupo proponente que no tiene en este caso capacidad de réplica nosotros hemos emitido

a la toma en consideración de la proposición de ley a pesar de las carencias e inconcreciones que en nuestra opinión recoge el articulado de la misma

sí que compartimos la dirección a la que apunta la proposición de ley un voto favorable a pesar también de que coincidimos con uno de los argumentos esgrimidos por el gobierno

debería ser abordado en la futura ley de empleo público el contenido de la propuesta debería ser incluido en la misma a través de enmiendas en el trámite de dicha ley de empleo público la propia proposición que se nos ha planteado y que hemos votado recoge en su disposición final que su articulado debe ser incluido en dicha ley

como decía nuestra coalición ha votado a favor de la toma en consideración por dos razones fundamentales en primer lugar porque la ley de empleo público está atascada

y no parece que al gobierno vasco le gusten demasiado los planteamientos que al respecto de la misma han venido haciendo los distintos sindicatos y tal vez esa sea una de las razones que hacen que no sepamos si esta ley va a poder ver la luz

el gobierno no parece estar consiguiendo los acuerdos necesarios con los sindicatos y sabe que está en una situación de minoría parlamentaria y eso en nuestra opinión está haciendo que la ley de empleo público decididamente seguramente si el gobierno hubiera sido capaz de hacer avanzar la ley de empleo público con los acuerdos necesarios con las centrales sindicales hoy no estaríamos proposición de ley en segundo lugar hemos votado a favor de la toma en consideración porque compartimos el objetivo de la misma la consolidación del sistema público

y que pasa por acabar con la estructural y desproporcionada tasa de interinidad existente este objetivo absolutamente necesario en nuestra opinión hace que nuestra coalición

en el articulado de la proposición la alta tasa de temporalidad de interinidad de nuestra administración pública es inaceptable y nos reclama tomar medidas también medidas legislativas como la que se propone con el objetivo de reducir de manera considerable la inestabilidad de las personas trabajadoras de la administración pública y garantizar tanto la estabilidad en los empleos públicos como mejores servicios

además se han incumplido por parte del gobierno los acuerdos y compromisos con los sindicatos en esta materia desde hace prácticamente una década manteniéndose similares tasas de temporalidad y eso debe hacernos ser proactivos a los grupos políticos a la hora de abordar esta cuestión pendiente y no escudarnos

colectiva que ya se dio por lo tanto hemos decidido votar a favor para a continuación en caso de ser aprobada que finalmente no lo ha sido

se pudiera desarrollar eficazmente y con respeto absoluto a la negociación colectiva

en todo caso creemos que la materia que propone la proposición debería estar incluida en esa futura ley de empleo público vasco tal y como la propia iniciativa que hemos votado recoge

en definitiva nuestra abstención se basa en una predisposición de nuestro grupo parlamentario a abordar legislativamente

en el empleo público y al retraso que trae la ley de empleo público vasco a pesar de esa consideración de falta de concreción en el articulado de la proposición

el consejo vasco de función pública en reunión de doce de noviembre

que previsiblemente incluirá las disposiciones para la consolidación de empleo que hasta ahora se contenían y se siguen conteniendo

en vigor para las masivas ope que están previstas a partir del año dos mil veinte en todas las administraciones públicas cuyo

todas las administraciones públicas vascas y no solo la administración general o gobierno vasco

que es una ley más sencilla y más técnica que puede permitir que esos

citadas ope y esta forma está propuesta esta forma que propone el gobierno entendemos que tiene las garantías necesarias que no tiene

ha tenido negociación sindical y ha tenido incluso apoyo mayoritario de los sindicatos y además cuenta con la seguridad jurídica que le otorgan los dictámenes favorables de la comisión jurídica asesora de euskadi cojua que constan en el expediente

que el grupo proponente tache de ineficaces las disposiciones de consolidación que recoge el proyecto ley de empleo público y sin embargo ahora proponga una réplica

defectuosa o sin las garantías suficientes y por otro lado también resulta llamativo el procedimiento que propone que es incluir que después esta su proposición de ley

el de las enmiendas y lo que resultaría sarcástico es que se acuse al gobierno incluso a los grupos que sustentan al grupo a un grupo que sustenta al gobierno de obstaculizar la tramitación de un proyecto ley del gobierno

y después haya que utilizar esta vía la vía de otra iniciativa para que esas disposiciones de consolidación

el ritmo de las iniciativas legislativas no es el mismo así la propuesta del gobierno cuenta con el aval de la cojua dice que se ajusta a derecho porque tiene antecedentes normativos porque se respeta la normativa básica el estatuto del empleado público y las de presupuestarias para los ejercicios del dos mil diecisiete y dos mil dieciocho en

y otras tasas adicionales y además se ajusta a la doctrina del tribunal constitucional y además

suficiente no establecen ni plazos ni porcentajes a diferencia de lo que sí establece

y una antigüedad mínima de ocho años para poder acceder a ellas cuestión

aumenta y que finalmente son los tribunales quienes determinarían lo que no se ha determinado en la norma como vemos todos los días en la jurisprudencia y además a nadie se le escapa esto no es ni voluntad ni cuestión de voluntad política que a la vigilancia del estado a la que estamos sometidos

y en concreto la actividad de la función pública vasca en particular y

ahora parece que la amenaza de recurso de inconstitucionalidad aumenta cuando en el parlamento español la ha conseguido representación un grupo

la técnica de recurso inconstitucionalidad pues de forma indiscriminada
y además la propuesta al gobierno amaitzen joan la diferencia

la negociación y apoyo sindical se entiende que muchos querrían más pero han entendido que por responsabilidad y realismo

que cientos volando con lo cual entendemos que compartimos el objetivo de la propuesta que hoy se sometido a toma en consideración de estabilizar empleo y de la necesidad de un marco jurídico nuevo no con el diagnóstico y entendemos que la y por qué carece de la propuesta actual carece de las garantías necesarias entendemos que el camino es la propuesta que previsiblemente vendrá en breve al parlamento

ha dicho recientemente no debemos tomar medidas orientadas a la austeridad lo que empeoraría la situación no debemos repetir los errores del pasado

incluso los organismos que defendían fervientemente fervientemente unas políticas fiscales que sacralizaron el control del déficit la deuda y el gasto público hasta tal límite

y han erosionado de manera evidente las políticas públicas

han visto que hay que reaccionar ya con políticas públicas expansivas y audaces que sirvan de acicate

desde euskal herria bildu venimos defendiendo desde hace tiempo que hay que darle una vuelta a las políticas fiscales y financieras que como decía el instituto de investigación económica de berlín

en sí mismo sería un error fundamental ahorrar cuando la economía se debilita solo incrementa

hacer una gestión pública responsable controlar el déficit la deuda y el gasto son acciones que deben sostener las políticas públicas que sirvan para generar desarrollo en la economía y atender las verdaderas necesidades sociales

y no puede ser un lastre o una camisa de fuerza

de nuestro país como se debiera son herramientas el déficit son herramientas y no deben ser el objetivo principal de las políticas públicas deben servir para responder a los retos económicos y a los retos

uno de los principales objetivos de los últimos gobiernos del estado ha sido convertir la extrema austeridad fiscal una política que se ha demostrado fallida en una obligación legal para ello el primer paso fue la reforma del artículo ciento treinta y cinco de la constitución con agustidad

pactada por el partido socialista obrero español y el pp en el dos mil once que dio prioridad al pago de la deuda por encima de cualquier otro gasto público y después en el dos mil doce el gobierno del pp aprovechó su mayoría absoluta para aprobar la ley orgánica de estabilidad presupuestaria

que es la plasmación legal de ese artículo famoso ciento treinta y cinco esta ley

estrangula las posibilidades de desarrollo de la economía vasca la aplicación de esta ley por los sucesivos gobiernos del estado

en valor las potencialidades del marco del concierto económico por parte de los distintos gobiernos vascos también en las cuestiones del déficit y de la deuda y de la regla del gasto es

europa tiene un marco de estabilidad lo sé lo conocemos marco que hay que cambiar sin duda alguna pero no endosen a europa lo que es responsabilidad de madrid y de vitoria europa define un marco a los estados y en este caso el estado español

ha decidido por su cuenta cómo intenta cumplirlo al parecer éxito la verdad reservando para la administración central los mayores márgenes tanto de déficit como de deuda europa habla de superávit estructural o de equilibrio del límite al ratio de la deuda

sesenta por ciento y del valor de referencia valor de referencia para el gasto que indica la tasa de crecimiento del gasto público a la que tienen que aproximarse

berez europak definitzen duena y me explico

y no a cada una de las administraciones públicas no se aplica mientras el estado tenga abierto un procedimiento de déficit excesivo procedimiento por cierto que ha tenido abierto el estado español hasta hace bien pocas fechas y a diferencia del estado español

no se aplica siempre al no ser un objetivo su incumplimiento no tiene consecuencias sancionadoras a diferencia del estado español

del objetivo a medio plazo por lo tanto la regla del gasto español no es exactamente la regla del gasto de europa

se lo dije al consejero pongamos en práctica nuestra autonomía financiera y exijamos al estado las herramientas que nuestra economía tiene para responder con solvencia a lo que viene

no va a bastar pero parece que no va a poder ser hoy parece que hoy no es el día a pesar de que hemos hecho un intento un verdadero intento de acercar posturas ustedes pnv y partido socialista no se han movido ni un ápice los partidos que sostienen al gobierno

pidiendo a otras instancias y no actuar

haciendo reclamaciones sobre mayores capacidades de inversión en actos públicos y no sentarse a trabajar

que impulse el gasto y las inversiones públicas que tanto hacen falta para cimentar el desarrollo económico y el futuro

vasca les hemos puesto encima de la mesa una propuesta con clara voluntad de acuerdo porque creemos firmemente que este es un tema un acuerdo de país pero han decidido quedarse donde siempre mantener el discurso de que no se puede hacer nada más de que este es el marco establecido y ya está

pero ustedes prefieren seguir como siempre al parecer

y con esta proposición que no es la primera que debatimos a este respecto

en esta cámara creo que tratamos de avanzar en esa democratización de los ingresos y los gastos públicos dije en esta misma tribuna el uno de marzo de dos mil dieciocho hace ya año

como no podía ser de otra manera pero quiere también una estabilidad presupuestaria que no esté reñida con la inversión social

dirijan se destinen a mejorar la vida de la ciudadanía y sí tenemos que amortizar deuda y sí

pero en elkarrekin podemos tenemos claro que si la dicotomía fuera entre mantener la educación pública y gratuita y de calidad la atención a la dependencia

la deuda debería esperar un poquito porque no queremos que en nuestras instituciones

el déficit social al déficit financiero y no tenemos que echar la vista muy atrás para ver que durante todos estos años los gobiernos y las instituciones locales han realizado recortes que se han cebado con la gran mayoría social de la ciudadanía

dirán que no quedaba otra que recortar y otros dirán que esos recortes

pero la cuestión es que ahora en la actualidad tenemos la oportunidad de mirar al futuro para que no se repitan los mismos errores del pasado tenemos la oportunidad

que de los errores se aprende y sé que a veces es frívolo hablar de errores para referirnos a políticas de austeridad a recortes en definitiva que se han llevado por delante

de personas pero repito tenemos la oportunidad de enmendar a la totalidad los años de gobierno del señor mariano rajoy y de poner las políticas públicas al servicio de la ciudadanía y ya no es que lo diga elkarrekin podemos o que lo diga la señora pinedo como lo ha dicho anteriormente es que es el propio

su error al exigir una austeridad que liquidó el crecimiento y que llevó a millónes de familias a la vulnerabilidad a través de recortes injustos y por eso nuestra apuesta ante una situación de crisis económica tiene que ser el fortalecimiento de la inversión pública que permita generar empleo en la economía que permita además mediante el gasto público orientar nuestra economía hacia los retos del siglo veintiuno hacia una economía con un horizonte verde

y una economía de digitalización y por eso el reto que tenemos aún en la actualidad es aún más amplio que aquel reto que teníamos en el año dos mil ocho

y es que todos los datos nos muestran que estamos en la antesala de una crisis

podemos hablar aquí de demanda externa podemos hablar de demanda interna podemos hablar de ahorro o podemos hablar de creación de empleo me da igual da igual qué variable económica escojamos de cual hablemos que todas y cada una de ellas se han ido revisando a la baja

que afrontamos un año dos mil veinte y años seguidos o años siguientes en los que tanto las empresas

van a ser más vulnerables de lo que han sido en este año dos mil diecinueve pero es que además tenemos que tener en cuenta que nuestra ciudadanía va a tener que afrontar esta situación

de las que la afrontó en el año dos mil ocho y para muestra tres ejemplos bien sencillos en primer lugar la tasa de desempleo de la actualidad casi triplica la tasa de desempleo de años anteriores a la crisis

en segundo lugar las tasas de pobreza y desigualdad social se han incrementado notablemente la tasa de personas que se encuentra en situación de pobreza relativa ha crecido un veinte coma dos por ciento en los últimos diez años y la tasa de las personas que se encuentran en situación de pobreza grave ha aumentado un sesenta y cuatro coma nueve por ciento en tan solo diez años y en tercer lugar el veintiuno coma cinco por ciento de las familias de euskadi no puede ahorrar ni un solo euro al mes

solo puede ahorrar menos de doscientos euros al mes es decir

en euskadi se ha quedado sin el colchón con el que afrontaba la crisis de antaño durante esta década

y tendrán que afrontar este nuevo periodo de incertidumbre sin ese escudo vital que es el de tener algo de dinero ahorrado para imprevistos

queda claro que hay que tomar medidas hay que tomar medidas desde lo público que protejan a las personas que aquí vivimos hay que tomar medidas que permitan proteger a las familias

ante las turbulencias de la economía mundial pero además tenemos un desafío que ya es indispensable afrontar

que tenemos como país para el siglo veintiuno y llegamos tarde a este desafío más vale tarde que nunca pero esto no podemos dejar pasar más tiempo tenemos que coger el toro por los cuernos y plantear soluciones para conseguir

para afrontar la transición energética que precisa y nuestras familias y para que acabemos de una vez por todas con la euskadi

que se materializa en una evidente brecha social y territorial en los próximos años para conseguir la estabilidad presupuestaria harán falta recursos

recaudación pero esos ingresos no podrán conseguirse de cualquier manera deberán ser obtenidos de forma justa donde quienes más tienen paguen más

y de la igualdad de oportunidades en un país llevan años diciendo y escribiendo manifiestos

de francia o de alemania que quieren pagar más impuestos

es el que paga menos y euskadi o en euskadi pese a que los ricos no lo digan también deberían pagar más

netos al mes paga un diecisiete por ciento una persona con un patrimonio superior a doce millónes de euros solo paga un dos por ciento y es por ello que en los próximos años necesitaremos seguir avanzando

fiscal pero es que por la necesidad de la justicia fiscal no solo aboga elkarrekin podemos o no solo aboga euskal herria bildu también ha hablado de esa necesidad el propio consejero azpiazu en varias ocasiones en las que ha afirmado que aún queda camino por recorrer

europea en cualquier caso también conviene que no nos engañemos mientras tengamos encima la espada de damocles de la ley orgánica dos barra dos mil doce de

será difícil que los límites de déficit de deuda y de gasto respondan a las necesidades de la ciudadanía sabemos que la ley dos barra dos mil doce es una camisa de fuerza que nunca tuvo que ponerse para recortar a las personas que peor lo estaban pasando por eso nuestro grupo considera que es ya el momento de quitárnosla de encima para que podamos usar las herramientas

de nuestro autogobierno en favor de la gran mayoría de nuestro país somos conscientes también de que la reforma de la ley dos barra dos mil doce no puede ser llevada a cabo desde euskadi pero somos conscientes también de la importancia de que este parlamento muestre su disconformidad con esta ley injusta y manifieste la necesidad de reformarla por eso

de la cámara para que apoyen la transacción que hemos alcanzado con el grupo de euskal herria bildu en esta cuestión eskerrik asko

gracias señora presidente asistimos a un debate

y un tanto sorprendente especialmente por la postura de los grupos que apoyan al gobierno que incluso algunos se olvida de que llevan año y medio gobernando en españa

y digo demagogia fiscal y financiera porque a ver nosotros somos partidarios de seguir en el euro

y nos digan verdad que las normas de estabilidad presupuestaria y el pacto fiscal europeo pues haya que incumplirlo pero nosotros somos partidarios del euro somos partidarios de seguir en la unión monetaria sí sí sí señora pinedo sí y luego me sorprende más

que los cuatro grupos que son socios en casi todas partes incluido en madrid

prácticamente lo mismo pero votan separado y me voy a explicar porque es sorprendente que tanto el pnv como el partido socialista rechacen las políticas extremas de autoridad que han estado en vigor durante

apoyado por el partido nacionalista vasco el que llegó al pacto fiscal en europa porque la crisis económica estaba a punto de llevarse por delante al euro

que se reformó y que esa reforma decía que había que aprobar la ley orgánica de estabilidad presupuestaria que es la que está vigente

ahora a ustedes no les gusta eso es correcto

pueden plantear que la unión europea modifique el pacto fiscal pueden plantear que la unión europea modifique el tratado de estabilidad coordinación y gobernanza de la unión y pueden plantear la modificación del artículo ciento treinta y cinco de la constitución española y mientras ustedes que están en el gobierno de españa no hagan eso no sé a qué viene aquí que voten que están en contra de las políticas

y b la siguen manteniendo desde el gobierno de españa apoyados por esos señores que también por cierto dicen lo mismo que ustedes

paradójico paradójico y digo que el debate este es falso porque y bueno y lo del gobierno es que es para nota o sea se llamaba nueva hoja de ruta fiscal oiga y en la enmienda del gobierno la palabra fiscal aparece

la palabra impuestos aparece en algún párrafo ninguno ninguno

los socios del gobierno presentan una enmienda que no hace referencia al tema del que se trata porque estos señores lo que nos plantean es subir los impuestos y el gobierno

desayunamos con que el señor azpiazu dice que abren la puerta a eliminar el impuesto de patrimonio

cuál es la política fiscal de este gobierno si es que tiene alguna si es que tiene alguna

que está y ha planteado ya la recentralización fiscal que por lo visto ahora al pnv le parece fantástico de los nervios que el gobierno de españa tenga todas las competencias fiscales en las citadas comunidades autónomas verdad

con el voto del pnv cuál es la política fiscal del pnv con esta propuesta atraer que vuelvan los que han dejado de pagar aquí que el pnv se haya podemizado pues

lo que se hace es decir aquí cada uno puede decir una cosa yo estoy asistiendo aquí a bildu poniéndoles a ustedes a parir porque no pactan con ellos tal pero es que plantean lo mismo el primer párrafo es igual y el segundo párrafo es igual que hay que modificar la ley orgánica de estabilidad pues modifíquenla

y tenían esa mayoría para hacer por qué no lo hicieron por qué no lo hacen

por qué no lo hacen en las políticas de nos dice la señora

tenemos un margen de sobra o sea el señor sánchez cada vez que manda un proyecto de presupuestos a bruselas se lo devuelven diciendo ha vuelto a suspender usted

es el hecho que significa que usted tiene más gastos que ingresos

estoy seguro de que usted no se gasta más dinero del que ingresa

y no sé por qué pretende que los demás que los demás vascos gastemos más dinero del que no tenemos por qué

me habla de alemania oigan los problemas de alemania son por las guerras del señor trump contra los aranceles y con la guerra de los aranceles que ha planteado a todo el mundo ahora me habla de draghi de guindos y de todos y qué han dicho todos

que los países de la unión que no tienen demasiada deuda

y segundo que inviertan más ahora bien este gobierno su inversión qué es comprar acciones que cotizan en bolsa a propuesta de bildu y de podemos

lo que aprobaron el otro día eso es la inversión

lo fiamos todo a que crezca la demanda interna porque las exportaciones

para incrementar esa demanda interna que los ciudadanos puedan consumir más que los ciudadanos tiren de la economía cuando usted tiene un superávit en dos años y medio de dos mil millónes de euros que le sobran al gobierno vasco

se les subió los impuestos a los ciudadanos especialmente a las rentas medias y bajas

que no sean estos los que siempre pagan sí son los que siempre pagan

que están todos en madrid no se han ido ya a madrid qué pagan aquí los ricos aparte de que los ricos ricos en fin creo que el personaje más rico de españa que vive en galicia a ver yo no sé si tendrá sueldo lo dudo

y que por ese sueldo cotice por el irpf pero bueno las propuestas del señor azpiazu

vamos a subirles a los ricos que paguen impuestos y así estamos como estamos hombre y la injusticia social que plantea usted señor bollain

que no existe ningún país del euro ninguno

oigan ni en grecia ni en grecia que era su referente ni en grecia

nosotros hemos hecho una enmienda y además es una enmienda que va en coherencia con lo que plantea este gobierno con los presupuestos que nos ha traído hay que favorecer la demanda interna oiga pues baje el irpf a las rentas bajas y medias bájeselos

dos años y medio vamos a hay que incrementar las inversiones ochocientos millónes de euros menos trae este presupuesto que nos ha traído este gobierno es un presupuesto inferior al del dos mil dieciocho

en el dos mil dieciocho para el dos mil veinte más del cincuenta por ciento del dinero disponible va a ir a pagar sueldos de funcionarios

qué medida ha adoptado este gobierno ya que estamos la economía va para abajo qué medida trae qué medida plantea fiscal económica de inversión

que nos va a sacar de pobres qué medida plantea

y su enmienda en un debate que supuestamente era fiscal pues resulta que de la fiscalidad no existe pero no es de extrañar que no exista dado que efectivamente

bildu los socialistas vascos junto con los nacionalistas vascos hemos hecho una enmienda hemos planteado una enmienda de totalidad de manera que instamos al parlamento a rechazar aquellas políticas de austeridad extrema que habían estado en vigor durante muchos años en la unión europea

en clave economicista sin tener en cuenta las consecuencias sociales para los colectivos más vulnerables en esta última crisis económica que fue además una crisis social una crisis financiera

se impuso a la política y dejó en el camino paro cualificado paro no cualificado incrementos exponenciales de situaciones en riesgo de exclusión social

el estado de bienestar las políticas que se adoptaron en europa por la crisis que aconteció fueron debatidas en esta cámara a través de iniciativas sobre cumplimiento de objetivos de déficit en el país vasco sobre adaptación a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera

iniciativas sobre requisitos para desarrollar una política presupuestaria equilibrada y sostenible iniciativas sobre las medidas necesarias ante los datos de recaudación fiscal del año dos mil dieciséis y en esta undécima legislatura en la que estamos ahora hemos debatido iniciativas sobre qué hacer con el excedente de recaudación sobre la reforma fiscal

sobre las medidas del gobierno vasco para responder a los nuevos retos es decir ni es nuevo ni es de ahora sino que viene de muy lejos y en todos los debates siempre hemos hecho referencia a la calificación de las medidas de austeridad provenientes de europa

unas políticas impuestas desde una visión económica y financiera pura y dura sin tener en cuenta la necesidad de adoptar medidas de protección del estado de bienestar aquellas políticas se impusieron en los momentos más críticos más duros

y adaptándose con más o menos acierto por parte de las instituciones europeas

los diferentes estados europeos hoy no estamos en los prolegómenos de una crisis como la que pasamos hace unos años estamos ante un ciclo de desaceleración de la economía

las del año dos mil ocho dos mil nueve las políticas no tendrán aquel cariz de austeridad extrema y dependerá también de quiénes vayan ganando los pulsos en el banco central europeo

que se endurecerán más o menos las medidas que se aplicarán no solamente para europa sino para todos los estados y también pretendemos los socialistas vascos con nuestra enmienda que se aborde desde el principio de responsabilidad una nueva política europea

el control del déficit público y las necesarias medidas de reactivación económica para la generación de empleo está bien que ante un escenario de desaceleración

por parte de las autoridades europeas como ha sido el caso y euskadi también ha tenido en cuenta esas posibles nuevas formulaciones planteando en los presupuestos para el año dos mil veinte

potenciando además el desarrollo económico y el empleo manteniendo y reforzando la inversión pública y todo ello todo ello en el marco de la estabilidad presupuestaria

además de contar con los instrumentos económicos que nos son propios en euskadi en ese planteamiento de los presupuestos generales de la comunidad autónoma vasca para el año dos mil veinte y esas acciones se marcan según las directrices económicas para el presupuesto de euskadi

de un débil avance del crecimiento económico en dos mil diecinueve y en dos mil veinte y una revisión además a la baja del crecimiento que se debe principalmente a alemania porque su demanda externa se estima menos dinámica de lo esperado

además el asunto del brexit del que no podemos olvidarnos provoca una elevada inyección de incertidumbre en el entorno europeo y también interviene la política monetaria europea

bajos los tipos de interés durante dos mil diecinueve y durante dos mil veinte y porque va a aplicar un importante paquete de estímulos económicos ante el debilitamiento de la economía europea algunos de los instrumentos que baraja la autoridad monetaria son los recortes de tipo de intervención

y la compra de bonos públicos aquella que costó muchísimo muchísimo lograr en los primeros años de la crisis no obstante de la política monetaria es cada vez más pequeño y por eso se insta a los países miembros a que dinamicen las políticas fiscales en euskadi en el ámbito de los ingresos

en euskadi venimos de una reforma fiscal del dos mil trece si se acuerda señor damborenea creo que usted también participó

buscando una mayor adaptación de los impuestos a la coyuntura económica en la que vivimos esos últimos ajustes creo recordar que también participó el partido popular aquello dio también estabilidad institucional y permitió un incremento

al sostenimiento de los servicios públicos y a cuestiones que son claves para que el crecimiento económico en euskadi se produzca y también haya una mejora y un crecimiento del empleo y ha sido además en esta legislatura en la que hemos tenido un pleno monográfico sobre fiscalidad con planteamientos y resoluciones de amplio consenso

en dos mil veinte toca evaluar los resultados de ese ciclo de la reforma fiscal que comenzó en dos mil trece y seguramente se producirán nuevas propuestas de cambio buscando al menos por parte de los socialistas vascos impulsar y favorecer medidas de crecimiento económico y de competitividad sin perder de vista la cohesión social

de justicia social y de una fiscalidad progresiva y distributiva pero en política fiscal también hay que tener en cuenta el gasto público y en ese ámbito cabe poner en valor que los proyectos presentados para los presupuestos de dos mil diecinueve y en dos mil veinte por parte del gobierno vasco se contemplaba

en torno al setenta y siete por ciento del presupuesto un gasto público que los socialistas vascos hemos orientado además prioritariamente a impulsar la reactivación económica

a salud y a políticas sociales el gasto público se ha dirigido a la ejecución de las acciones para cumplir los objetivos incluidos en los quince planes estratégicos que se han aprobado en esta legislatura planes estratégicos destinados a avanzar

que esté cohesionada socialmente y que sea equilibrada territorialmente y el último punto de nuestra enmienda de los socialistas vascos y nacionalistas vascos

de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera flexibilizándola para aplicarla con eficacia a esta realidad de euskadi para garantizar también la sostenibilidad de las cuentas públicas respetando las reglas de estabilidad porque ustedes proponían la propuesta de euskal herria bildu era derogar la ley y con derogar la ley no avanzamos no hacemos nada derogamos la ley y

cómo nos vamos a tener luego han visto la nuestra y han decidido que bueno que parecía que se ajustaba más a determinados parámetros y por eso proponían en la primera parte reformar la ley

pero miren los socialistas vascos votamos en contra en el año dos mil doce de esta ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera porque entendíamos que aquella ley debía formar parte de un acuerdo de país como fue el tema de la reforma de la constitución

se sumó a aquel acuerdo de país pero no realizaron la misma gestión con esta ley

en el congreso de los diputados llegar a un acuerdo de país con esta ley orgánica y nosotros veíamos en el dos mil doce que era necesario un amplio consenso

porque la situación era difícil porque era compleja no solamente económicamente sino también social y financieramente

aquello truncó los primeros años de vigencia del estado del bienestar porque lo reformaban porque realmente hubo recortes recortes sustanciales en las políticas públicas

aquella ley en los primeros años fue incapaz de reactivar el crecimiento económico en el momento de su aplicación y hemos planteado esta reforma de la ley orgánica de estabilidad presupuestaria

el rigor de unas cuentas públicas con medidas a su vez que sean incentivadoras de la actividad económica y mantener y reforzar el estado del bienestar pero para eso hay que hablar hay que debatir y hay que negociar con quien realmente tiene la sartén por el mango y es la primera instancia

de los acuerdos o posibles políticas financieras económicas y monetarias y esa es europa eso es europa eso no es el gobierno del estado eso es europa a posteriori una vez debatido y negociado determinados acuerdos

y las comunidades autónomas podrán con sus instrumentos negociar equilibrar situaciones y adaptarlas a sus realidades pero nunca antes de haber obtenido una reforma de lo que es la política europea y esa es la dificultad

esa es la gran dificultad ustedes ponen el carro antes que los bueyes y eso entonces no funciona

el cambio o la reforma de las políticas europeas no sé a quién se lo están realmente instando desde luego a europa no ni en su propuesta original

el debate de hoy es un debate recurrente lo suele traer euskal herria bildu cuando en el horizonte ya asoma la negociación presupuestaria lo hizo en el dieciséis en el dieciocho y en este diecinueve en esta pnl que estamos debatiendo hoy

que a bildu le gusta el gasto independientemente de la tesitura económica le gustaba un aumento de gasto en el dieciséis en el trece en el doce y le gusta y propone un aumento de gasto en el diecinueve independientemente de la deuda

del europeo del mundial el gasto le gusta y la segunda es que

su proposición criticando las políticas de austeridad extrema que ha llevado a cabo en algunos países la unión europea cosa que también nosotros en primer punto criticamos

sitúan el balón en el tejado del gobierno solicitando subrepticiamente con mucho eufemismo y con una calculada ambigüedad que se incumpla la ley

que se esquive con instrumentos que no existen le voy a leer literalmente lo que usted pide que seguramente le sonará

con j un objeto jurídico no identificado no sabemos no sabemos lo que es después habla usted

objetibo batzuk edukitzea defizit esparruan ez zaigu txarto iruditzen por qué porque se habla mucho

como grecia por ejemplo pero también habrá que mencionar que previamente esos mismos países tuvieron vivieron una situación de extremo gasto por tanto

como el post ambas situaciones son entendemos nosotros negativas y aterrizo ya sobre el fondo del asunto hay dos instrumentos que se contemplan en la ley de estabilidad presupuestaria del dos mil doce que es el objetivo del déficit

se habla en un cierto clima de bilateralidad entre gobierno y que varía dependiendo del contexto económico

cargar más las tintas porque sí es cierto que es una regla que decide por nosotros dónde invertimos en superávit y es cierto señor damborenea usted en su proposición nos pide que aumentemos

en inversiones financieramente sostenibles seguro que si hubiéramos tenido otra regla de gastos seguro que si la ley que ustedes aprobaron en el congreso hubiera sido otra hubiéramos tenido más inversión por tanto

es una regla de gasto pensaba igual es un café para todos en la mejor tradición

igual para una comunidad que tiene una deuda del doce por ciento como para una comunidad que tiene el doble o el triple y por tanto sí pedimos que se flexibilice

una notable capacidad de gasto en este caso de inversión que sería lo que deberíamos acometer en una política procíclica cuando estemos porque el año que viene vamos a crecer el dos por ciento lo recuerdo porque parece que vamos a caer señor damborenea usted propone un cóctel que a primera vista podría parecer atractivo no dice usted bueno bajamos los impuestos subimos la inversión y todo ello manteniendo el déficit cero eso sí para dotarle de coherencia a su propuesta añade vamos a limitar el gasto público

a su propuesta porque la propuesta de reforma fiscal ya la han hecho y la han explicitado en sendas propuestas y vamos a empezar a sumar son

en recorte de irpf cuatrocientos millónes de euros cuatrocientos

sí cuatrocientos millónes de euros a pagar a la prima

más inversión pública si actualmente para el año veinte estamos previendo una inversión pública de

y después por supuesto más recursos para las familias para fomentar la natalidad ayudas a la conciliación

como ha defendido su compañero mejorando las condiciones laborales de las personas empleadas públicas no y todo eso cambiando el ratio de distribución vertical

y todo ello en un marco de déficit cero que nos obliga la ley para el año que viene

le digo yo a usted demagogia fiscal y financiera demagogia fiscal y financiera la suya

qué es lo que no le gusta al pp de las políticas del gobierno vasco y lo primero que me viene a la mente

cuatrocientos cuarenta y nueve millónes de euros vamos a suponer que usted suprime la mitad de la rgi porque me imagino que a los pensionados

una ayuda complementaria vamos a quitarles doscientos veinticinco

en total y estoy inflando los datos a su favor no al mío son cuatrocientos millónes de euros dígame cómo cubrimos todo el hueco que hay

que es la suma de todo lo que ustedes proponen si es que son coherentes con lo que dicen

que la propuesta fiscal de casado que es aún más agresiva que la suya no es realista y por tanto eso

señor damborenea que cuál es la política fiscal del gobierno la política fiscal del gobierno ya la conoce porque la hemos ejercido durante los cuarenta años que llevamos de democracia o al menos hemos influido un cierto

es mantener el estado de bienestar que tenemos actualmente sin ahogar el sector público

del impuesto de patrimonio bueno el impuesto patrimonio si se elimina y es una

habrá que pensar en que siga habiendo existiendo una cierta progresividad

especialmente se ha dirigido a los partidos que sustentan al gobierno solo decirle que no es que no gaste más de lo que tengo es que no me dejan gastar ni lo que tengo

eduki beharreko intentzioak madrilera joaten denean mire yo una vez le decía al señor consejero a madrid no se va

y en una hora volver con los mismos límites de déficit y de deuda

se va a ejercer una bilateralidad real real no de postal y hacer que dentro del concierto económico se respeten la autonomía fiscal y financiera que algunas veces se les olvida que tiene la comunidad autónoma vasca mire

loca y demás pero es que no es eso lo que hemos puesto encima de la mesa yo he dicho en todo momento que iba a ser dentro de una gestión responsable y usted sabe

controlar el déficit sí amortizar deuda

pero cuidar a nuestros ciudadanos también también señor arruabarrena también y ese es el problema que ustedes algunas veces se les olvidan las cosas que hay que hacer

pero insisto hay que ir a madrid a hablar y no me vengan ustedes con que esto es un marco europeo porque yo conozco perfectamente el marco europeo perfectamente

todo lo conozco perfectamente pero la realidad es

en primera instancia por una ley posterior que es la que pone los límites a las comunidades autónomas y a otros órganos de ámbito local y es esa ley la que dice que esta comunidad autónoma tiene que tener esas limitaciones y luego es el gobierno de turno el que les pone numerito

el que se guarda para sí mismo las mayores capacidades de endeudamiento y de cumplimiento del déficit que encima no lo cumple porque es que es

está todo el día diciendo a los demás que cumplamos y ellos no cumplen mire para el dos mil diecinueve punto de cerrar en relación al déficit

de muy probable le recuerdo que son diecisiete comunidades autónomas

ninguna comunidad autónoma con previsiones de cumplir y en relación a la deuda hay una o dos comunidades que quizás a lo mejor como diría aquel quizás a lo mejor si sale el sol se acercan al límite de deuda y ustedes me dicen que la ley está para cumplirla miren señores del pnv y señores y señoras del partido socialista yo no he dicho en ningún momento incumplimiento de ley porque he hecho un ejercicio de acercamiento a su postura

porque creía que este es un tema de país es un tema de país

una decisión porque los retos a los que se va a enfrentar en este país son retos tremendos y no podemos estar haciendo y no puede ser que un día sí y otro también este gobierno se lamente de que no puede hacer más no puede ser tomen la iniciativa es lo que se les está diciendo

porque aun cumpliendo el marco europeo ustedes saben que hay margen se puede hacer se puede hacer

pero no quieren hacerlo porque a ustedes insisto la camisa de fuerza no les tira de la sisa porque están cómodos con esa camisa de fuerza porque están

ese es el problema que tienen ustedes y luego me dicen de su enmienda mire no hace mucho

que se rechazan las estrategias que tiene como objetivo impedir vaciar y condicionar el desarrollo del autogobierno vasco está el pnv de acuerdo con esto sí o no

porque esto también es una estrategia del gobierno del estado que impide el desarrollo de la comunidad autónoma vasca el desarrollo y ustedes están otra vez con eso miren

que a eh bildu le gusta el gasto no sabe qué le gusta a eh bildu

eso es lo que le gusta a eh bildu no se trata de gasto en cualquier momento o no que hay que gastar evidentemente que hay que gastar pero yo se lo he dicho rigor claro que sí soy la primera que defiende el rigor presupuestario pero un rigor presupuestario propio

una administración que incumple sistemáticamente con su rigor presupuestario

a tí para que sus números salgan un poquito más decentes en europa porque esa es la realidad los números de españa no son tan malos gracias a las comunidades autónomas y a los organismos locales esa es la realidad pero ustedes están ahí cómodos
pues sigan cómodos ahí pero no vuelvan a decir que no da para más amaitu mesedez

legebiltzarburu andrea al señor damborenea decirle que

gran mayoría han sido responsabilidad vuestra y que incluso sus alcaldes sus alcaldesas

de una ocasión entonces vemos aquí en un sentido que ustedes le echan los trastos al partido socialista vemos que el partido socialista le echa los trastos a ustedes lo de siempre no pero

no nos ponemos a trabajar y el problema del partido socialista en este caso es que ustedes se tragaron todo lo que vino de europa sin cuestionarse si era bueno para la ciudadanía o no se lo tragaron todo lo que vino de europa

que no estamos dice que no estamos en la antesala de una crisis económica

pero que no necesariamente estamos ante una antesala de una crisis económica el problema señora corcuera bueno no sé por qué usted dice eso

que la situación de la ciudadanía en euskadi es mucho peor de lo que era en el año dos mil siete que tenemos una deuda del gobierno vasco que se multiplica por diez respecto a lo que había aproximadamente en el dos mil siete un desempleo que se multiplica aproximadamente por tres respecto a los años anteriores de la crisis

que aumenta un sesenta y cuatro coma nueve por ciento y un ahorro en el que el cincuenta y siete por ciento de las familias casi seis de cada diez no pueden ahorrar ni doscientos euros al mes por lo tanto hay un peligro real de que estemos en la antesala de una crisis económica porque vemos cómo nuestra demanda externa

crecer en negativo que se decía entonces es decir que vamos a vender menos de lo que

nuestro crecimiento económico se va a basar principalmente en una demanda interna que también se está debilitando entonces pues no sé

qué tiene en contra de la enmienda transaccional a la que hemos llegado euskal herria bildu y nosotros una enmienda

muy cerca de un acuerdo en este caso pero no han querido moverse nada

han dado una vuelta entera y han seguido por la misma línea a mí me gustaría que usted nos dijera qué tienen en contra del primer punto que es vuestro del segundo punto que es que el parlamento vasco manifiesta la necesidad de reformar la ley orgánica

respondan a las necesidades de la ciudadanía vasca y que tienen en contra de bueno con el objetivo de responder a los retos que tenemos en euskadi

hoja de ruta fiscal es que no sé por qué no hemos sido capaces de llegar a un acuerdo se han empecinado en quedarse con lo vuestro y no han salido de ahí

luego también demagogia en este sentido las justas porque ha dicho que a nosotros nos da igual el déficit a ver yo no estoy diciendo que ingresemos diez mil y gastemos treinta mil y tengamos un déficit de casi de tres por ciento del pib

de que el déficit son herramientas para hacer política también desde la responsabilidad pero son herramientas que se han usado y que habrá que seguir usando y lo decía claro en mi discurso que como lo dije en marzo del dieciocho

responsabilidad presupuestaria sí pero que no esté reñida con la inversión social

y que seguiremos amortizando deuda pero que si existe una dicotomía entre escuela pública de calidad

ayudas a la dependencia ayudas de emergencia pues igual la deuda tiene que esperar algún año

por lo tanto no sé por qué no hemos sido capaces de llegar a un acuerdo cuando estaba tan tan tan fácil muy fácil aun así

cuando se conforme si se conforma el próximo gobierno en el estado español

para que podemos flexibilizar esta ley y podamos dar realmente un margen pero me da mucha pena que no se haya llegado a un acuerdo porque estaba muy cerca si desde el gobierno hubieran tenido un poquito más de voluntad para realizarlo eskerrik asko

los cuatro grupos que plantean lo mismo porque usted quería ganarle y ser más de izquierdas que los de izquierdas

que estaba sentado también allí cómo que vienen de europa quién acordó eso ustedes

buena oposición hace si no fuera porque está usted en el gobierno vasco y en el gobierno de españa lo demás su discurso estaría muy bien señor arruabarrena

regla de gasto yo se lo dije el otro día el consejero

en los últimos cuatro años lo ha incumplido el gobierno vasco tres y este año también la va a incumplir

ninguna ahora me alegra

la propuesta fiscal del partido popular porque es evidente que es la única que está encima de la mesa porque cuál es la del partido nacionalista vasco la que un día habla el diputado general de vizcaya la que otro día dice el de guipúzcoa

al señor azpiazu en cada momento y si quiere usted vamos a hablar de nuestra reforma fiscal pero no haga caso de los números del señor azpiazu

ni respecto a nuestra propuesta fiscal ni siquiera a los que le presentan el presupuesto que usted va a votar a favor

yo no sé por qué usted

que es más o menos el superávit anual que tiene este gobierno este año va a tener más

por lo tanto no le afectaría ahora segundo

de su propuesta inicial de pnv y partido socialista se bajó el impuesto de sociedades

sí o no sí no o sea que bajar impuestos a veces supone que se recauda más no vale bien

que lo fiamos todo a que crezca la demanda interna y eso cómo se hace subiéndoles los impuestos a los ciudadanos como plantean ustedes porque ustedes son las únicas propuestas que tienen hasta en este presupuesto no está el subir el agua

subir el agua el canon del agua a los ciudadanos aparte

verdad la subida del gasoil que ha traído mucho empleo mucho gasto social sobre todo en el paro

verdad es una forma de incrementar el gasto social nosotros no estamos de acuerdo con eso por qué a usted le molesta

el dieciocho por ciento como paga en madrid y no más del veinte por ciento como está pagando aquí por qué tiene que pagar

que las rentas bajas que son las que más pagan en toda españa las vascas

o a las medias que son las que más pagan en toda españa se les rebaje el irpf

oiga esto del concierto económico antiguamente era pagábamos menos impuestos se suponía que gestionábamos mejor

ahorrábamos más y podíamos pagar menos impuestos pero claro como era gestión el pnv

incluida la etb que no son ciento treinta millónes son ciento cincuenta millónes mírese el presupuesto que la subida es fantástica

tenemos vigente la que votó el partido popular con el partido socialista por cierto y con su abstención digo por recordárselo ahora sí nosotros sí tenemos esa propuesta fiscal usted dice el gobierno vasco tiene margen de maniobra

o no subimos los impuestos en el trece para poder mantener el gasto social y cuando hemos batido todos los récords de recaudación del irpf y usted tiene superávit por qué no puede volver a la situación que estábamos en el trece por lo menos para las rentas medias y bajas

a usted le parecerá que no le salen las cuentas a mí las cuentas que no me salen son las que presentan ustedes que siempre consisten en que los de siempre porque subir el agua en fin a los ricos no sé si les afectará mucho pero a todos los demás sí

sí gracias presidenta y brevemente porque creo que el planteamiento

euskal herria bildu con podemos no tiene absolutamente nada que ver ni con la propuesta original de euskal herria bildu ni con la enmienda de adición que había planteado

planteaba la derogación de la ley dos barra dos mil doce la derogación

nos vamos a la reforma que es lo que planteaba la nuestra por ahí han ido las cosas señor bollain no se lo digo porque como usted me hacía una serie de comentarios vamos a ver

evitar la catástrofe esta que nos ha relatado desde el año dos mil siete qué hacían sus correligionarios

quienes estaban en ese mundillo de la política algo harían algo harían

que la propuesta de incremento de deuda desde el año dos mil nueve al año dos mil doce

para tener más recursos por qué fue pues léase la hemeroteca y se informa bien yo ya se lo comenté el otro día pero aprovecho la ocasión porque hablaba usted

le he visto aquí ahora cree que ante las prioridades sociales la deuda debía esperar un poquito ahora es un poquito pero es que antes era esto es una catástrofe porque nos hemos endeudado no sé cuántos miles

vamos a ver estamos ante el poquito o estamos ante el mucho ante el muchísimo es que hay que aclararse verdad hay que aclararse según cómo vengan las tomas no vale decir una cosita o la contraria al menos

ante los temas porque no estamos hablando de tonterías ni de cosas que no tengan luego repercusión en la vida de la ciudadanía y entonces hay que ser un poco más rigurosos

decía usted que los socialistas en españa en el congreso hemos tragado vamos carros y carretas pues no y se lo vuelvo a recordar y así luego usted también se lo vuelve a mirar

que votamos en contra todos los socialistas en el congreso de los diputados ante esa ley vale

dichosos y encantados de la vida de que se pusiera en marcha

bueno pues eso no tragamos ni con carros ni con carretas ni con ruedas de molino el señor damborenea venía un poco en plan

sacamos algo en claro y además es que décimos que los grupos que sustentan al gobierno no saben

y yo se lo vuelvo a repetir porque usted estaba en el dos mil trece

usted estaba en el dos mil trece usted firmó un acuerdo presupuestario y un acuerdo de reforma fiscal y usted estaba también usted estaba también

esa es la política fiscal que estamos aplicando déjese de qué dicen

la política fiscal que se aplica y que estamos con el presupuesto dos mil veinte es la que usted aprobó la que usted refrendó con su firma

o no pero por eso me parece que su intervención ha sido la de la pataleta porque no tiene otra explicación no tiene otra explicación señor damborenea

que otra cosa porque claro nos ponemos en el hecho de que este gobierno

da bandazos y camia sin rumbo bueno su política hoy

para los presupuestos de dos mil diecinueve y no tiene nada que ver nada que ver y usted lo sabe mejor que yo con el tema de la política fiscal que estemos aplicando nada

pero no nos haga a todos pensar que en fin que somos

por ponerlo en unos términos justos en esta cámara decirle a bildu en los diecinueve segundos que me quedan ustedes no se creen lo de la hoja de ruta ustedes tienen dos iniciativas para el tema

cuál es la norma de gasto que queremos imponer y el tema del déficit tienen dos iniciativas

mucho tiempo y no las han traído aquí a debatir hoy nos vienen como que la hora hoja de ruta fiscal va a salvar todo el tema no señora usted es tan consciente como yo de que o empezamos a cambiar la política en europa o los estados tendremos que avenirnos y hacer con las herramientas que tenemos lo que buenamente podamos si la política europea no somos capaces de negociarla y adaptarla a determinadas coyunturas económicas sociales y financieras que han cambiado y que no vienen de igual manera que en la crisis del dos mil ocho

de los países europeos tendrán que hacerse cargo de una política europea de la que ellos también habrán participado creo que seremos capaces de negociar algo la situación es distinta y por lo tanto

diferentes y adaptados y creo que podremos conseguirlo si tenemos amplitud de miras como al menos yo creo al menos confío que en la política la haya amplitud de miras
para modificar las cosas y adaptarlas a las coyunturas del momento gracias eskerrik asko corcuera andrea euzko abertzaleak arruabarrena jauna zurea da hitza

contexto político en el que se está atacando el estado de las autonomía basado en bulos y en mentiras podemos compartir y podemos recalcar cada vez que

el hecho de que las autonomías son y especialmente la vasca que es la que menos

ahí podemos estar de acuerdo también estamos de acuerdo en que hay que reformar la ley de estabilidad presupuestaria para dotar de una nueva regla de gasto que flexibilice

de todo lo que es cíclico quiero decir que estamos en la antesala de una crisis de momento estamos en un enfriamiento y de momento el año que viene vamos a crecer un dos por ciento digo estamos en la antesala de una crisis evidentemente lo que no sabemos dentro de dos años de tres años o de cuatro años

hacer una política procíclica y en el momento en que empezamos a caer hacerla anticíclica y para eso qué es bueno tener un endeudamiento bajo y euskadi tiene el menor de endeudamiento del estado un doce por ciento seguiremos

para que cuando vengan realmente maldadas podamos hacer política procíclica y luego anticíclica comentaba en su intervención que por qué no hemos entrado en la transaccional se lo he explicado y además le he leído cuál es exactamente el texto aipatzen da zeuen erdibidekoan eta

hoja de ruta planteamientos sobre todo hay leyes y nos atenemos a leyes y hay que cumplir las leyes y la solicitud que hace hoy

es que se flexibilice la ley que es lo que se puede hacer que es lo que está en nuestra mano al menos solicitarlo y señor damborenea mire yo le compro su iniciativa

la inversión y déficit cero lo que pasa que tendrá usted que comentar de dónde recortamos y yo le he hecho un cálculo y usted me dice no la reforma de irpf no es de mil quinientos millónes de euros porque se hace

que es su propuesta fiscal sus propuestas en favor de la conciliación

cómo recortamos un tercio de presupuesto para el año que viene un tercio claro que sí

es que lo que dice usted es una barbaridad y yo no sé si es usted consciente o lo suelta yo creo que sí es usted consciente porque lleva muchos años en esta cámara y seguro que el cálculo lo tiene hecho en la cabeza

fiscal en el año dos mil veinte el que está actualmente en vigor lo pactamos con ustedes y de hecho ya comentamos que la evaluación habría que hacerla en el veinte y la propuesta en el veinte y así lo haremos haremos propuesta fiscal basada en un principio de equidad lo he dicho antes que tenga un equilibrio entre mantener una fiscalidad

pero suficiente para mantener el estado de bienestar que tenemos actualmente eskerrik asko eskerrik asko arruabarrena jauna

que convendría recordar al inicio de este debate por un lado no tienen dueño eso significa que pertenecen a quien quiera disfrutarlos y por otro lado no son un bien económico entendido de forma académica en la medida en que al no ser un bien escaso se supone que no tienen valor económico pero sin embargo

y precisamente por eso precisamente por eso son capaces de proporcionar beneficios

y a todas las empresas de un país y en la medida en que benefician a la sociedad y a la economía de un país en este caso de euskadi nos permiten avanzar

es necesario poner las condiciones adecuadas para ello y a eso se dirige la moción que presentamos hoy hay que adecuar el marco legal hay que establecer un apoyo financiero

hay que articular un control técnico y administrativo adecuado para permitir para poner las condiciones para que se desarrollen el marco legal hasta ahora era sumamente restrictivo teníamos ese injusto e indebido impuesto al sol que limitaba

doscientos cuarenta y cuatro barra dos mil diecinueve sobre autoconsumo eléctrico de alguna manera despeja ese panorama por lo tanto nos queda la cuestión del apoyo financiero el apoyo financiero mínimo que precisa

para avanzar en este sentido y ahí las instituciones obviamente tienen que implicarse no estamos hablando de un apoyo financiero desmedido sino simplemente del mínimo para que complete la rentabilidad creciente que a día de hoy ya tienen las energías limpias en el mercado

y si ponemos las condiciones necesarias y dejamos el protagonismo a la sociedad civil que a día de hoy ya está actuando en esta materia a través de cooperativas a través de proyectos de autoconsumo que ya se están poniendo en marcha que incluso se ponían en marcha cuando tenían el lastre indebido del impuesto al sol iremos

que ya nos han marcado otros países yo sé que el señor grajales seguramente no le sorprenderá

la distribución de las energías limpias distribuidas en alemania más del cincuenta por ciento en manos de particulares el cuarenta por ciento en menos de particulares el once por ciento en manos de baserritarras el siete por ciento en manos de gobiernos municipales y regionales y el nueve por ciento en manos de industrias y comercios es decir

de la energía solar que se produce hoy en día en alemania es de modo distribuido pero además cuando hablamos de protagonismo de la sociedad civil tenemos que tener clara una figura que nos viene ya

ciudadanas de energía unas comunidades ciudadanas que se han aprobado por una directiva

de este año y que tendrá que ser traspuesta antes de finales del año dos mil veinte por el gobierno de españa las comunidades ciudadanas de energía son asociaciones son cooperativas son organizaciones sin ánimo de lucro que están orientadas

que son redes controladas por miembros locales dedicadas a la generación distribuida de energía y que realizan actividades de gestor de red de suministrador o de agregador

el panorama de cómo entendemos no solamente la producción de la energía sino cómo se distribuye esa energía hasta los puntos de consumo y las ventajas

igual que de la producción de energía descentralizada es hoy en día la mejor alternativa para el insostenible sistema energético actual beraz

gracias señora presidenta señorías señor lehendakari consejeros nuestro grupo ha hecho una de adición a la iniciativa presentada por elkarrekin podemos sobre energía renovable descentralizada porque básicamente el concepto de la moción lo compartimos pero nos parece que hacía falta dos puntos que nos parecen importantes a tener en cuenta el parlamento vasco pedimos en nuestra enmienda de adición insta al gobierno de españa a trasponer con carácter de urgencia la

electricidad directiva que pretende articular un marco jurídico acorde al proceso de descentralización de los sistemas y también instamos al gobierno vasco a incluir

actividad económica en el ámbito rural fomentar la eficiencia energética la limpieza de nuestros bosques y minimizar el riesgo de incendios hablaba el señor becerra del sol y el viento están las olas está el agua está la biomasa

creo que hay bastantes factores para poder desarrollar energías renovables descentralizadas hablaba de la normativa que se ha aprobado

limpia de la unión europea se completó en junio con la publicación de

la directiva dos mil diecinueve barra novecientos cuarenta y cuatro sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad

que son relativos al mercado interior de la electricidad

de unión europea para la cooperación de los reguladores de energía también para garantizar la seguridad del suministro eléctrico en definitiva un paquete que nos marca

esto o cómo marca desde bruselas y luego está lo que los estados miembros tendremos que

adaptadas a la nueva realidad energética con un uso masivo de fuentes y un consumidor cada vez más activo la directiva incorpora novedades importantes en su articulado definiendo actividades sujetos hasta ahora inéditos

el objetivo como les decía de la directiva es articular un marco jurídico acorde al proceso de descentralización de los sistemas eléctricos también incorpora disposiciones relativas a la integración

se recoja esto y tengamos que incorporarlo ya en cada estado miembro y en las comunidades autónomas directiva con reglamentos que invitan a los ciudadanos a convertirse

y que animan a las empresas a contribuir activamente en este proceso y para que esto se pueda dar y tenga éxito se necesita tener una legislación clara y completa respaldada por el desarrollo normativo correspondiente

mucha inversión económica y para que esto no genere incertidumbre para que esta inversión económica se haga con toda la regulación exigible es por lo que creo que la directiva se tiene que transponer con carácter de urgencia sí que tenemos hasta final

mucho mejor porque esto genera como digo que sean mucho más proactivos los inversores y que se pueda poner cuanto antes por lo tanto eso es inevitable y les hablaba de la biomasa yo quiero recordar que ya hace como cinco o seis años participó en esta cámara desde departamento

para informarnos de cuál es el volumen de biomasa que tenemos en la comunidad autónoma del estudio que había hecho

de cómo se comunicó a cada ayuntamiento las potencialidades que tienen en biomasa

como digo por ayuntamientos está en los cajones de los ayuntamientos ha habido un ayuntamiento

vive solo un ayuntamiento que ha desarrollado aquello tenemos un potencial ya sé que es una actividad más humilde que no tiene grandes ceros que no hablamos de grandes volúmenes pero es

energía kilómetro cero lo tenemos en la puerta de casa

de los generadores para usar biomasa por lo tanto lo tenemos todo en casa

bien pero es que tenemos mucha biomasa y además hay necesidad de ordenar todo eso que tenemos en nuestros montes

que no faciliten que corran las enfermedades como hemos tenido ahora un problema y lo tenemos quiero decir que no es lo más clamoroso del mundo seguramente seguramente a la señora consejera le gusta hablar

veinticuatro megavatios placas solares tanto volumen económico

pequeñas pero es una energía de kilómetro cero y creo que debemos de apostar

y es por lo que nosotros hemos incluido este punto porque creo que estamos haciendo poco

y que nos puede proporcionar unas alternativas importantes en el ámbito rural tanto para los espacios públicos como para los privados y creo que
deberíamos de poner más interés en este ámbito nada más muchas gracias eskerrik asko lópez de ocariz andrea

gracias presidenta y buenos días a todos una vez más debatimos en este pleno en torno a las energías renovables

y la necesidad de la apuesta por las mismas el reconocimiento de las carencias en euskadi aunque también el compromiso

en este asunto compartía con el señor becerra lo que apuntaba en la justificación de su iniciativa cuando afirmaba que el desarrollo de las energías renovables es una asignatura pendiente

en todos los documentos del gobierno relativo a lo que tiene que ver con la industria y con el futuro económico en las estrategias

una apuesta por este gobierno por invertir en la energía del futuro pero como digo quizás hemos hablado durante mucho tiempo y ha faltado quizás una determinación

a medida que el sector energético se transforma crece el consenso de que la energía sostenible es un catalizador para lograr la mayoría de los objetivos de desarrollo sostenible

la manera en que las personas interactúan entre sí y con sus proveedores de energía el pasado mes de octubre el gobierno vasco anunció que solo contratará energía cien por ciento verde en todas sus instalaciones y por tanto aquí hay un dato positivo

aunque también es cierto que no podemos olvidar los datos de dependencia energética en euskadi que no terminan de mejorar la necesidad de inversión de energía renovable

mayor por parte de todos porque es verdad que el gobierno vasco tiene un papel determinante también lo tenemos la ciudadanía y por supuesto y sin olvidarlos

en el pleno de control reconoció que quizás euskadi está haciendo esfuerzos menores de los que necesitáramos para llegar a los objetivos planteados por europa

mayores y más intensos y de ahí la necesidad de apuestas presupuestarias en lo que debatiremos en el próximo mes y que afectará a la política energética de euskadi

se afirma que los desafíos vienen ligados a los conceptos de transición energética o ecológica uno de los conceptos que planteaba el señor becerra

intervención hace unos minutos en el año dieciocho se superan los nueve millónes de euros para promover el uso racional de la energía y la ejecución de proyectos de

la apuesta por la energía renovable debe pasar de las tribunas a los hechos concretos las exigencias europeas las conocemos y seguimos estando alejados hoy parece que hay un acuerdo importante en lo que tiene que ver con esta iniciativa como digo ojalá pasemos de acordar en esta tribuna a poder ver la realidad fuera planteaba una enmienda de adición el partido popular en la que se refería a exigir al gobierno de españa la trasposición de una directiva europea

no hay más que ver todo lo que ha hecho el gobierno de españa durante la pasada legislatura en el tema de la energía por lo tanto no hay ninguna duda que lo que sea bueno para la energía

se ha debatido mucho en este parlamento efectivamente creo que de la biomasa podíamos hablar pero sí podíamos haber implementado mucho más la iniciativa original del señor becerra porque hay muchas cosas de las que podíamos hablar como pts de energías renovables

cada una de las posibles energías renovables que probablemente necesiten el impulso del gobierno vasco

recordar que no hace tantos meses se aprobó en este parlamento un pacto por la energía que

el gobierno está trabajando y es ahí donde está la consecución de la política energética de este país

porque de ahí dependerá el futuro económico de euskadi porque es verdad que durante mucho tiempo se ha hablado de energía pero cada vez está más cerca el hecho de que el desarrollo de las energías renovables forme parte del futuro económico de este país y como digo y para terminar es fundamental la implicación del tejido industrial vasco que es un tejido industrial muy determinante tenemos

y que desde luego sin su implicación además de la administración y de la ciudadanía pues será más difícil poder ver resultados por tanto quedarme con lo positivo de la votación

la política energética de este país está en nuestras manos y que me quedo con aquel pacto de la energía que propuso el señor

me parece que hoy viene al caso esta frase al menos si la intención de la moción de hoy es el desarrollo del autoconsumo y la generación distribuida de energía

es vano si el objetivo es otro como me temo entonces me callo y le digo que el esfuerzo es vano no porque lo que se dice en la moción no sea necesario ni carezca de sentido al contrario suscribimos su discurso al cien por ciento si no que es vano porque a estas alturas del partido

sobre todo estoy hablando del pnv ya ha dejado claro en su acción que no ya es que no sea impulsor del autoconsumo de la generación distribuida

sino que es uno de sus impedimentos y digo a estas alturas del partido porque la discusión sobre la promoción del autoconsumo viene de lejos en esta cámara

la que ha sido mientras no se le ha obligado a nada como pasa en esta moción pues adelante con los faroles en esta moción no se habla de hacer ningún plan no se habla de ningún plazo no se habla de ninguna dotación y volvemos a la declaración de intenciones a los impulsos sin compromisos a los refuerzos no determinados ni cuantificados ahí evidentemente el pnv

yo creo que es un buen indicativo haciendo un pequeño repaso

tenemos que empezar el dos mil trece en la que una transaccional a partir de una pnl de euskal herria bildu que fue apoyada

decía que en caso de que entrara en vigor el real decreto aquellos reales decretos del pp que dejaban las renovables

como el suelo después del paso de atila se pedía al gobierno vasco que analizara las propuestas concretas

llegaron esas propuestas concretas no llegaron

hubo otra pnl transaccional también con los votos a favor

del pnv incluso de upyd en la que se decía se pedía que

en el plazo de seis meses un informe que analizara las repercusiones de normativa de autoconsumo y hablaba de un marco normativo propio

llegó ese informe tampoco llegó ese informe unos meses después a finales de dos mil quince en un pleno de control la pregunta

arantxa tapia decía que la base sobre la que se estaba trabajando era un reglamento

no una ley se presentó ese reglamento no se presentó ese reglamento y ya un poco hartos de los incumplimientos hubo una moción transaccional de euskal herria bildu y el partido socialista de euskadi en el que

legislatura pasada que se diera cumplimiento íntegro a lo que ya se había aprobado anteriormente

a la elaboración de una ley que regulara el autoconsumo evidentemente cuando llegó una obligación mayor

entonces el pnv votó en contra voto en contra y claro ahí es cuando

para no hacer nada efectivo y para rematar todo aquello se bloqueó la ponencia de generación eléctrica y se la dejó morir sin siquiera hacer un dictamen

y el ocho de marzo del año pasado aquí se aprobó y por unanimidad con el voto de todos de todos los presentes que antes

y la distribución compartida se ha presentado

pues no han sido estos todos los incumplimientos que ha habido en materia energética evidentemente no

después de haberla pactado con la creación del fondo o con los inicios de los trabajos de un plan territorial sectorial

que también se acordó por ley y no se está trabajando así que en este contexto señor becerra entenderá que nuestra desconfianza vaya in crescendo en este tema y realmente nos extraña

una moción en el que no hay plazos no hay dineros no hay planes concretos entendemos que visto el histórico pues no es momento de relajar el nivel de exigencia entendemos que estamos en la recta final de la legislatura y apoyar la moción de hoy sin sujeción de plazos ni nada es

es permitir una vez más una escapatoria al pnv para que parezca que va a hacer algo que tiene un compromiso cuando ni lo ha tenido

en autoconsumo o en generación distribuida como saben todos los presentes nik uste dut nahiko argi geratu zela zuk duela asko ez urriak

hábil ejercicio de lanzamiento de tinta de calamar lo mezcló todo para explicar que el gobierno hace cosas y habló de compra centralizada de energía renovable habló de los cinco megavatios de fotovoltaica que tiene el eve de bidelek de biometano

de biomasa de hidrotermia y y en ese batiburrillo habló de fomento de autoconsumo y de apoyo a las comunidades ciudadanas de energía literalmente dijo que estamos impulsando nuevos proyectos y nuevas oportunidades en cuanto a comunidades energéticas y también nos dijo nos dijo que tendrán la oportunidad de verlo en los presupuestos pero en los presupuestos por mucho que uno los mire de arriba a abajo

a las comunidades energéticas no hay referencia no hay ni una sola referencia en todos los presupuestos y no hay nada que sea reseñable cualitativamente

es más los presupuestos al igual que la señora tapia lo que nos muestran es que ya no es que no se vaya a impulsar lo que usted está proponiendo

aparentemente el pnv no tienen nada claro ni siquiera lo que es el autoconsumo mucho menos la generación distribuida porque la principal apuesta la principal apuesta en este apartado en los presupuestos de dos mil veinte se hace con la participación del cadem del centro para el ahorro y el desarrollo energético minero

de la que estamos hablando el autoconsumo comunidades energéticas etcétera es más yo creo que ese día quedó incluso claro que

porque hablaba la señora tapia de que después del decreto

ya está el marco normativo para puesto para las comunidades energéticas eso es lo que dijo cuando en realidad este marco viene de las directivas europeas

y la otra a la que ha hecho referencia la señora lópez de ocariz

en el que estamos y además nos quieren convencer de que en base a unas supuestas regulaciones que no existen porque no se ha traspuesto va a haber unas partidas reales que después no existen

pues yo creo que las cosas se redondean y quedan claras y hoy habrá un apoyo mayoritario a esto pero evidentemente no hay ninguna intención de hacerlo yo creo que a estas alturas la apuesta del pnv es muy evidente ya se ha dicho también por el gas fósil y no y mucho menos por la generación distribuida y el autoconsumo así que entendemos que hoy con esta moción no se avanza no se avanza sino que más bien el gobierno intentará lavarse la cara sin

fosilista esta sí bien determinada y bien presupuestada como se puede ver en los presupuestos por eso decía por eso le decía que si el esfuerzo era sincero pues va a ser vano y llevará a la melancolía aunque eso sí

si esta moción se enmarca dentro del baile nupcial de las aves presupuestarias pues entonces eso ya se me escapa entonces estamos hablando de otra cosa y allá cada cual sabrá dónde está no y si no le queda claro

por qué cree usted que en esta materia por primera vez en toda la legislatura los partidos que apoyan al gobierno le van a apoyar su moción sin siquiera haber hecho una enmienda con lo puntilloso que han sido durante todos estos años entendemos que no podemos

pero queríamos dejar aquí nuestra queja y los términos de nuestra queja por lo que viene no por no estar de acuerdo evidentemente con

la generación distribuida y el autoconsumo como usted bien sabe sino porque entendemos que no podemos avanzar si no se aprieta un poco más y se deja

bai mila esker legebiltzarburu andrea le puede usted responder señor becerra pero

porque estábamos de acuerdo con lo que planteaban ahora si sale usted hoy aquí y no utiliza lo del greenwashing le da algo verdad

la palabra de moda en fin decía usted recordaba efectivamente que hace aproximadamente año y medio que tratamos en este mismo pleno sobre el autoconsumo

ante esta cámara nuestra apuesta activa por el autoconsumo y la generación distribuida y lo seguimos haciendo otra cosa es que no compartamos al cien por ciento su visión porque usted tiene la costumbre de venir aquí

ya está mal pues mire es que igual efectivamente tenemos una visión diferente de lo que es la generación distribuida ahora ya venir a mezclarlo

también nos da para saber que subir un punto porcentual en los objetivos que tenemos que cubrir de aquí a dos mil treinta supone generar quinientos setenta

ya me contará a usted si eso lo podemos hacer solo con una fórmula o con la otra yo creo que igual

en fin tomarnos seriamente esto y conocer nuestras capacidades nuestras limitaciones y todo lo que hay que poner en el asador en este caso pero como digo hace año y medio ya lo dijimos y ahora lo mantenemos es inútil ponerle puertas al campo y que el autoconsumo iba a crecer iba a pasar a ser una realidad importante en la configuración del sistema eléctrico en el futuro cercano

y así nos lo está demostrando el tiempo reclamábamos entonces con ustedes

en consonancia con las directivas europeas que ya para entonces abrían la puerta a un autoconsumo responsable que cubriese el consumo basal y con una regulación que diese estabilidad legislativa

para entonces como ya se ha dicho los autoconsumidores ya eran reconocidos a nivel de la unión europea

que les diese el derecho a generar consumir almacenar y vender su propia energía desde entonces la situación ha cambiado en nuestra opinión a mejor

y el estado y no olvidemos que esta cuestión está sometida a la legislación básica el estado también ha dado pasos importantes en la dirección en la que esta cámara

ustedes el grupo socialistas vascos y nosotros

en el que se cambia el paradigma y se fijan las bases del autoconsumo por fin lo que veníamos exigiendo el autoconsumo se posiciona como un elemento importante en la transición energética siendo uno de los

el uso de renovables en la producción de electricidad y para incrementar la capacidad de decisión

entre otras medidas eliminando los cargos a la energía autoconsumida aquello que se conoció en su día como el impuesto al sol y finalmente el gobierno de españa aprueba el real decreto doscientos cuarenta y cuatro barra dos mil diecinueve

un decreto con novedades importantes en compensación de excedentes en autoconsumo colectivo y en trámites administrativos

y que esa situación nos da pie para trabajar más y mejor por la transición energética en desde y para euskadi

si ya se venían haciendo cosas como por ejemplo dotar al país de redes inteligentes sin las cuales es impensable poder avanzar en la dirección correcta

la primera actuación tras la aprobación del real decreto ha sido facilitar y comunicar el nuevo proceso de tramitación de la autorización administrativa

el sistema telemático de tramitaciones para este tipo de instalaciones lo cual ha supuesto un avance importante en la solicitud de ayudas que se han atendido pasando de doscientos kilovatios en dos mil diecisiete

en bi mila hemeretzi este nuevo marco

se está trabajando en el impulso de nuevos proyectos que aprovechen esta nueva regulación favorable junto con el impulso a la creación del consumidor activo en euskadi siguiendo las directrices marcadas por la comisión europea

a través del área de generación distribuida y gestión de la demanda del eve presentará en breve nuevas iniciativas para el desarrollo de comunidades energéticas en las que se pueda compartir energía y optimizar la gestión de oferta y demanda energética a nivel local

a consumidores domésticos para que adquieran la condición de consumidores activos

con gestión de generación distribuida de demanda y almacenamiento eléctrico el impulso de la creación de la figura del agregador de demanda como agente activo en el sistema eléctrico y por qué no decirlo nuevos modelos y nuevos nichos de negocio para nuestras empresas

unas instalaciones de autoconsumo que hibriden soluciones de acumulación eléctrica renovable y almacenamiento eléctrico con especial

es uno de los ámbitos de trabajo principales que tenemos por delante por todo ello hoy daremos nuestro apoyo a la moción que ha traído el señor becerra la compartimos plenamente en su letra y en su espíritu y como una cosa es predicar y otra dar trigo

el ente vasco de la energía aparte de los programas de ayudas que ya tiene en vigor adicionalmente ha incluido en el proyecto de presupuestos de dos mil veinte una partida de diecisiete millónes de euros para inversiones en este tipo de instalaciones en el ámbito de aplicación de la ley de sostenibilidad energética aparte lógicamente

junto a terceros cumplimiento de esta ley nos dará pie a integrar en nuestro sistema la generación distribuida

hacia un modelo energético más sostenible que nos permita compatibilizar el desarrollo de las energías renovables

bueno decía la señora rojo que la dependencia energética de nuestro país es alta y en eso estamos de acuerdo

energía eólica solar o de otro tipo como hasta ahora ha venido haciendo el último informe de seguimiento de la estrategia energética dos mil treinta dice claramente los indicadores se encuentran muy lejos de las metas que se han establecido para el año dos mil treinta no podemos estar esperando a que el gobierno impulse grandes instalaciones centralizadas que por otra parte como ya he dicho tienen un potencial limitado en el país y por lo tanto cuando nos vienen avances de europa y en esto coincido con la seña lópez de ocariz lo suyo es

esos avances lo antes posible y por lo tanto al primer punto que usted propone como enmienda de adición nuestro grupo lo va a apoyar sin duda no podemos esperar a diciembre de dos mil veinte en esta cuestión

admito que en mi discurso inicial he mencionado solamente el sol y del viento y que hay otras energías renovables

pero bien es cierto que estas son las que han alcanzado un nivel de madurez a nivel económico y financiero y en cuanto a explotación usted propone

que sin embargo desde nuestro punto de vista requiere una reflexión adicional es cierto que es una energía renovable es cierto que en euskadi puede ser una energía kilómetro cero pero también es verdad que no siempre es una energía sostenible en función de cómo sea la explotación y demás

ya es más cuestionable eso no quiere decir que estemos en contra sino que yo le animo a que ese debate lo tengamos de forma diferenciada

requiere más matizaciones que el sol y el viento y por lo tanto a esa cuestión nos abstendremos pero como digo no estamos en contra yo

con la cantidad de veces que hemos desarrollado iniciativas conjuntas vea en esta iniciativa una intención de hacer greenwashing junto con el gobierno

no tiene objetivos ni tiene plazos y que no era ese el objeto de esta iniciativa nosotros no la planteamos

en nuestra interpelación efectivamente lo que nos propusimos fue una declaración

que diferenciase lo que la señora tapia había mezclado unas cosas con las otras lo que no le acepto es que diga que

junto con el gobierno no puede ser que todo lo que impulsen los demás lleve a la melancolía y lo que impulse uno sea impulso auténtico y verdadero porque yo no sé si usted tiene melancolía o no de cómo está yendo el pacto vasco sobre la energía que le compró el gobierno en la primavera pasada

que era muy difícil obligar a que el gobierno cambiase su estrategia a través de un comité de personas expertas pero precisamente porque ese comité de personas expertas es quien tiene que poner los objetivos

por no pisar el trabajo de las personas expertas y por no dejar en evidencia lo mal que está funcionando ese pacto vasco de la energía los motivos

es que en la primavera pasada cambia el marco normativo

que no potenciaban el autoconsumo eléctrico porque decían que la normativa no lo permitía se escudaban una y otra vez en esa cuestión pues bien en primavera cambia el marco normativo

y encima en junio se desarrolla la directiva de las comunidades ciudadanas de la energía por lo tanto nuestro grupo vio la oportunidad honesta

y a la vista de la respuesta de la señora tapia una moción una moción presentada sin ningún otro objetivo oculto y mucho menos presupuestario que el de vencer las excusas que nuestro grupo entiende que hasta ha presentado el gobierno para desarrollar la energía distribuida

desde luego nuestro grupo aún viendo las dificultades seguirá impulsando el pacto vasco de la energía seguirá impulsando mociones como estas

con plazos y objetivos concretos que vinculen más al gobierno ahora creíamos que era la oportunidad de hacer declaración conjunta que de alguna manera vincule a los grupos del gobierno en el desarrollo de unas energías que desde nuestro punto de vista en este caso la energía distribuida
tiene mucho futuro y sobre todo lo tiene de la mano de la sociedad civil y en eso estaremos eskerrik asko eskerrik asko becerra jauna

sí gracias señora presidenta bueno señor becerra me llama la atención ese retintín por la

o activar la generación de energía a través de la biomasa estamos hablando de una energía que

es mínimo tanto en su combustión como en su extracción si lo comparamos con el gas o con el gasóleo le digo el gas porque es la alternativa que el gobierno nos ha metido hasta aquí tenemos los pueblos llenos de conducciones de gas

me niego a utiliza el gas quiero utilizar biomasa y quiero tener

hombre quiero decir que creo que aquellos que queremos ejercer esta o poner en marcha una energía

la podamos hacer y que se potencie porque como le decía todos sus residuos y desechos podrán ser aprovechados energéticamente

se pueden reutilizar como abono con la limpia de los montes para obtener el producto minimizamos el riesgo de incendios qué pasa por qué castilla

tienen unos planes impresionantes para la implantación de la biomasa impresionantes ha cogido tal volumen de posicionamiento esta alternativa de energía en el ámbito rural no creo que sea nuestro territorio ajeno a esto qué condiciones o qué circunstancias se dan aquí que no se dan en otros sitios me gustaría saber y luego bueno su precio no un litro de gasóleo equivale a dos kilos de pellet en cuanto

sin embargo dos kilos de pellet pues nos cuestan cero coma veintinueve euros

un euro pues fíjese un setenta por ciento

y sí reduce riesgos de incendios forestales y plagas de enfermedades claro que sí porque esa limpia tiene que ser ordenada y controlada efectivamente efectivamente y como se está haciendo ahí tenemos un ejemplo un ejemplo

y de generadores de calor de última generación y qué nos pasa pues francamente nos pasa que como le decía antes

y que tenemos que utilizar un recurso que lo tenemos como le decía kilómetro cero y que habrá que impulsarlo

se hizo desde azti un estudio un estudio importante que valora además la producción

es barato y es como le digo kilómetro cero

bai eskerrik asko berriz bueno igual me he expresado mal yo para nada le estoy acusando a usted de hacer

lo que digo es que su moción para mí tiene un problema que es que le deja una

en lo que va a quedar esta historia pero bueno digo que para distinguir para distinguir las cosas y se lo digo porque

señor grajales más o menos ha quedado claro el gobierno está diciendo que esto ya está cumplido

ha dicho que el eve ya ha aumentado las ayudas que ahora va a haber diecisiete millónes de euros para todo este tipo de cosas

porque los diecisiete millónes de euros ahora hablo un poco más de ello no tiene nada que ver con la generación distribuida

y sí señor grajales el gobierno tiene un problema con entender lo que es la generación distribuida y usted dice que no me remito al proyecto de presupuestos del año dos mil veinte en la parte del ente vasco de la energía página veinticuatro que es lo único que dice el proyecto presupuestario sobre la generación distribuida y gestión de la demanda y habla de la participación del cadem

el proyecto de generación y se está refiriendo al proyecto de generación ekian

distribuida con lo cual no me diga a mí que ustedes no tienen un problema de comprensión con lo que es la generación distribuida cuando lo reflejan y es la única referencia que hay

están mezclando y usted una vez más ha hecho lo mismo porque usted ha dicho que ya se han aumentado las partidas para estas cuestiones que hay diecisiete millónes de euros pero a usted se le ha olvidado distinguir que en esos diecisiete millónes de euros hay ayudas

hay ayudas para comprar coches de gasoil y gasolina entonces

otra vez de todo ese batiburrillo de acciones que se supone que van a darnos eficiencia energética y ahorro

distribuida autoconsumo y comunidades de energía porque son cosas diferentes porque las comunidades de energía no tienen ningún reflejo en los presupuestos usted aquí ha dicho palabras y en el proyecto presupuestario viene reflejado lo que en principio van a hacer otra cosa es que lo hagan o no pero desde luego no está reflejado lo de las comunidades energéticas yo

defender la labor del gobierno pero yo creo que es importante entender

cuando habló de lo que había en renovables no habló de esos cinco megavatios que tiene el ente vasco de la energía en trescientos cincuenta instalaciones

distribuidas a lo largo de toda la comunidad pero se le olvida decir no que tiene

que supone que supone la posesión de doscientos megavatios de generación eléctrica en combustibles

y es a lo que se ha estado dedicando el gobierno durante todos estos años venir aquí con un montón de pequeños proyectos proyectos pilotos pequeñas inversiones y algunas ayuditas por aquí y por allá que no digo que no las haya si lo pone uno en comparación

la electricidad y lo que se está impulsando realmente cuando hace la comparación en escala y no en cantidad de proyectos es cuando uno se da cuenta de cuál es la verdadera apuesta de este gobierno

y que lo está haciendo bien pero luego cuando mira los datos y los datos los hemos ido pidiendo durante esta legislatura resulta que el noventa y siete por ciento

que se produce a través del ente vasco de la energía es a través de combustibles fósiles y un tres por ciento es a través de renovables noventa y siete por ciento fósil

hay cuarenta veces más dinero invertido en producción eléctrica fósil que en producción fotovoltaica por ejemplo entonces

la apuesta y el verdadero alma y el verdadero corazón y la verdadera intención es evidente por dónde va

cuando lo que nos viene a decir es que estamos hoy a un treinta y tres por ciento de consumo de gas

y la aspiración es que tenemos que subir a un cuarenta y dos por ciento evidentemente

pues claro que después cuando plantee los paquetes de ayudas

etcétera y también dedicará porque para todo hay un poco para repartir para decir que se ha hecho para todos llegará un poco

generación distribuida estudio para la implantación de seis instalaciones de autoconsumo evidentemente pero de qué escala estamos hablando yo creo que

que en vez de pensar y vender lo bien que se está haciendo yo creo que este gobierno más bien debiera de pensar por qué desde que el señor urkullu

la generación renovable en este país estaba en un siete por ciento hace siete años ya y sigue estando en un siete por ciento y por qué las emisiones de gases de efecto invernadero estaban

toneladas por cabeza año y ahora estamos en un nueve coma dos esa es la pregunta que tienen que responder por qué después de todos estos años en realidad los números gordos

buenos ya buen mediodía a todos vamos a ver miren

y les comunico de antemano porque he hablado con los portavoces de los partidos que sé que no va a salir aprobado no va a salir aprobado

la verdad no lo acabo de entender pero bueno es el juego de la política y vamos a hablar sobre el consejo escolar vasco

una cosa que les quiero decir es que para mí me parece un órgano fundamental porque todos los años prepara un informe que además es sobre todo un informe cuasi estadístico sobre todo

de cuantificación y nos da una radiografía de lo que pasa en los centros escolares y en todo el sistema escolar de euskadi desde luego nuestro grupo lo aprecia grandemente de él además se deducen y el informe asume bastantes las carencias que tenemos las carencias que tenemos por tanto vaya por adelantado

al consejo escolar de euskadi y a los informes que realiza yo les digo personalmente que a la altura de febrero o así lo vuelvo a leer y a la altura de septiembre preparando ya todos los temas para los periodos legislativos importantes lo vuelvo a leer pero

que tiene capacidad de mejora como todas las instituciones y el consejo escolar de euskadi también tiene gran capacidad de mejora y por tanto es a eso lo que nosotros queremos contribuir a su mejora no nos cabe la menor duda

y es un mérito que es un informe eminentemente técnico que debe estar redactado por técnicos eso desde luego lo asumimos

ahora bien vamos a su composición y lo que es en el plenario que es un órgano menos técnico y

es en la composición del plenario donde nosotros creemos que se podrían hacer mejoras y cuáles son esas mejoras vamos a ver permítanme que les lea la composición rápidamente tenemos cuatro personas de

tres de bige y tres de feguiapa que comprendo que para muchos de ustedes dirán qué es eso

de las asociaciones de padres y madres de alumnos tanto en la pública como en la concertada tres de ikasle abertzaleak y uno del sindicato de estudiantes cuatro por la administración educativa tres por parte de confebask tres miembros de comisiones obreras por los sindicatos dos miembros de kristau eskola como titulares

privados concertados tres de ela y uno de lab por el personal administrativo uno de la upv uno representando a las cooperativas

uno representando a los directores un técnico y luego aquí viene mi sorpresa un representante de urretxu uno de urnieta uno de santurtzi uno de astigarraga estos todos son políticos eh uno de baños de ebro

yo lo que no puedo entender es que eudel nombre a estos representantes de los municipios y no haya siquiera en el plenario

porque vamos a ver los municipios pueden tener ciertas competencias en educación son sobre todo competencias auxiliares competencias subsidiarias competencias de mantenimiento ahora reducidas pero

por ejemplo nunca he visto a estos representantes decir que no a un programa que en opinión de nuestro grupo es fundamentalmente injusto que es el programa udal laguntza por el cual en obras

muchas de ellas son obras de renovación de infraestructuras el competente que es el gobierno hace que cada ayuntamiento tenga que pagar un cuarenta por ciento de la obra yo como ayuntamiento nunca lo he entendido cuando he sido miembro de un ayuntamiento

yo lo llamo gobernu laguntza se trata de que los ayuntamientos ayuden al gobierno y a estos representantes municipales que aparecen en el consejo escolar de euskadi nunca les y que son políticos nunca les he oído alzar la voz contra este tema que a mí me parece un agravio ni les he oído alzar la voz contra otras cosas que hacen que son competencias

más gobernu laguntza entonces claro resulta que este consejo escolar de euskadi tiene presencia de políticos que se supone que representan a los municipios pero son de estos municipios que les he dicho

en materia educativa qué tendrán que ver el ayuntamiento de bilbao con baños de ebro o el ayuntamiento de donosti

poco poco pero bueno los nombra eudel y ahí están

un órgano como es el parlamento vasco como es el parlamento vasco que vamos a ser los que aprobemos o no primero que somos la representación directa de los ciudadanos

y que vamos a tener en nuestras manos aprobar documentos tan importantes sobre todo dos fundamentales para el futuro educativo de nuestra sociedad

y otras leyes y luego sobre todo la ley de presupuestos

del parlamento vasco y emanan por qué porque somos el primer escalón de la representación ciudadana

y resulta que en el consejo escolar de euskadi está urretxu pero no está el parlamento vasco está astigarraga pero no está el parlamento vasco me dirán sí pero esas personas están representando a los municipios de euskadi perfecto pero los municipios de euskadi como vuelvo a decir sus competencias en educación son muy limitadas y lo que sí hacen es asumir competencias impropias y yo no les he oído a estos quejarse nunca entonces digo yo si

están en el consejo escolar de euskadi por qué el parlamento vasco

cuando nosotros sí que vamos a tener que tomar decisiones fundamentales para el futuro educativo de nuestra sociedad como digo las sucesivas leyes de presupuestos la ley general de educación pero también otras leyes accesorias y estoy pensando la que aprobamos en esta legislatura que fue la ley de fp y ustedes me dirán yo hasta lo podría compartir

es un órgano fundamentalmente técnico y yo lo comparto eso es lo que es y eso es lo que quiero que sea por eso valoro tanto sus informes pero entonces

personas de carácter político que son concejales o ese tipo de personas en el consejo escolar de euskadi y el parlamento vasco no está y no estoy hablando ni de la permanente ni de las subcomisiones que se van encargando de cosas concretas

estoy hablando de en el plenario por lo menos que estuviéramos representados porque lo siento mucho pero creo que la capacidad de esta institución

es mucho mayor de la que tienen los ayuntamientos entonces si los ayuntamientos están yo pido que esté también el parlamento y

porque como les digo nuestro grupo estima altamente al consejo escolar de euskadi lo estima altamente

pero de estar por lo menos como testigos para dar fe del estupendo trabajo que hacen y no estamos y no estamos y luego también les voy a decir esto aquí ya voy a empezar a pisar charcos pero a mí por ejemplo me parece que

está sobrerrepresentada sobrerrepresentada lo cual puede ser beneficioso vamos yo personalmente

por qué porque creo que los trabajadores tienen que defender sus derechos es verdad pero claro a nadie le llamará se llamará aquí a espanto si digo que precisamente en educación

con los representantes sindicales no tanto porque defendieran

sino porque muchas veces han defendido modelos ideológicos modelos ideológicos que no me parece exactamente que es lo que tienen que hacer yo todavía en la última comisión

de un modelo ideológico no están defendiendo a los trabajadores y me contestó una cosa rarísima

habían metido también la vertiente política y que por tanto estaban legitimados a ver desde el sentido común un sindicato

han escuchado lo que les he leído hay una sobrerrepresentación clara y luego la consejera tendrá muchísimos problemas y

porque claro en este órgano y en otros se va a encontrar que hay ideologías que entrando por la puerta de atrás que es la puerta sindical

van a proponer modelos que no son modelos que estén

que es donde hay que consensuarlo en este parlamento y en cambio los grupos políticos que somos los que vamos a tener que consensuar la ley de educación

los presupuestos todo aquello que es vital para el desarrollo de la educación en nuestro país no estamos representados no sé pues me imagino que pues urretxu creo que es bildu no

pues me imagino que los de bildu confiarán mucho en que el señor de urretxu defienda los intereses generales de la educación en euskadi bueno pero es que yo me temo que no es así y ustedes defenderán mucho

que creo que es un representante del pnv defienda profundamente

sino los intereses de la educación en euskadi bueno nosotros no nosotros creemos que miembros de este parlamento no en las funciones técnicas

porque lo que hace valioso al consejo escolar de euskadi es su carácter eminentemente técnico pero que sí que en el plenario debiéramos estar presentes porque como les digo de aquí nace el consenso educativo

van a nacer de nuestro consenso las leyes que van a afectar a la educación y año a año los presupuestos van a permitir desarrollar esas leyes que hemos consensuado

nos lo van a aprobar este planteamiento pero como me ha dicho el señor damborenea

es que tiene razón gracias eskerrik asko

consigo expresar en no mucho tiempo porque entiendo que ni usted ni el señor damborenea

en lo que plantean en relación con la composición del consejo escolar usted recordará que en febrero del dos mil diecisiete el grupo parlamentario popular precisamente presentó una proposición de ley de modificación de la ley trece barra ochenta y ocho del veintiocho octubre de consejos escolares

que a través de esta ley se incluyese un representante de las cooperativas de enseñanza así fue además de otras modificaciones que también se realizaron porque se entendía que el caso de las cooperativas sí tenían y tienen un papel en el sistema educativo

se votó y se aprobó una ley que actualizó la configuración tanto del consejo escolar de euskadi

del dos mil diecisiete no de hace tanto tiempo además se incluyó una representación de las asociaciones de directores y directoras de centros educativos públicos

también se aprovechó para actualizar los órganos competentes para la designación de los representantes de las facultades de educación de la upv por parte del consejo de gobierno y el nombramiento en su caso de las cuatro personalidades de reconocido prestigio y para terminar

pero en ningún momento en ningún momento se convino por parte de ningún grupo parlamentario tampoco del partido popular

con la respuesta de que únicamente faltaban las cooperativas de enseñanza y nadie planteó tampoco el partido popular la inclusión en el consejo escolar de euskadi de representantes

como el órgano máximo de participación de los sectores sociales implicados en la programación general de la enseñanza no universitaria y de consulta y asesoramiento

en el ámbito educativo elabora dictámenes de las normas que regula la enseñanza e informe sobre la situación de la misma además ha de ser consultado sobre los grandes temas de educación como decretos planes como se hizo con el acuerdo para la educación

la ley trece barra ochenta y ocho de veintiocho de octubre de consejos escolares es una ley por la que se crearon órganos de consulta participación y asesoramiento en la programación de la enseñanza no universitaria y así se configuró en el consejo escolar de euskadi

de participación no de politización siendo en aquel momento el partido socialista el responsable de la gestión educativa cuando debatimos en el dos mil diecisiete la modificación de esta ley dije que entendíamos que el consejo escolar había cumplido su misión en informar a la administración

y fijando criterio como órgano plural e independiente

órgano plural e independiente de asesoramiento de la administración educativa y de participación de los sectores y esa afirmación

de todos los sectores de la comunidad educativa comunidad educativa repito que puedan contribuir y mejorar nuestro sistema educativo y este órgano tiene una representación que se mejoró con un agente de la comunidad educativa que no estaba que eran las cooperativas mejora sustancial en la propia actualización de la ley la participación es un valor en sí mismo un valor democrático

la participación es necesaria y un consejo que se rija por la autonomía de criterio que sea lo más autónomo plural e independiente posible y esto no sería así ni tendría autonomía de criterio si los partidos políticos formásemos parte de él el consejo escolar es autónomo por definición

un margen en el que moverse igual que nosotros tenemos el nuestro y voy a utilizar sus propias palabras para explicar por qué entendemos que no pintan nada los partidos políticos en el consejo escolar los partidos políticos como usted

tenemos nuestro espacio de competencia que es este parlamento al igual que lo tienen el suyo

las leyes educativas el acuerdo de bases las normativas los presupuestos

el sistema público de educación en este país por lo tanto dejemos a cada cual que trabaje en su ámbito correspondiente el consejo escolar en su ámbito de competencia y mantengamos la nuestra en el ámbito

la administración educativa junto con los agentes de la comunidad son quienes marcan la agenda de educación no metamos representación política que solo sesgaría esa autonomía del consejo e independencia que es uno de los valores con las que pregona el consejo escolar de euskadi y por esa razón y no por otra

tienen ya un papel asignado el de elección directa en este parlamento para sancionar aprobar o rechazar aquellas propuestas que haya hecho el departamento previa audiencia en todo caso del consejo escolar que emite en sus informes y que se tendrán en cuenta por la administración educativa

el de aprobar rechazar o modificar las propuestas legislativas y también los presupuestos generales de la comunidad autónoma y no el de interferir en las gestiones en las discusiones o en los informes que haga el consejo escolar de euskadi yo

me ratifico en que no tiene ningún sentido lo que ustedes proponen eskerrik asko pastor jauna elkarrekin podemos macazaga andrea zurea da hitza

pero le explico señora bengoechea el veinte de febrero del dos mil diecisiete su grupo presentó

escolares de euskadi una modificación que como ya contamos en la toma de consideración de la misma nos parecía insuficiente pero con la que estábamos de acuerdo la modificación de la ley trece barra mil novecientos ochenta y ocho del veintiocho de octubre como digo de los consejos escolares de euskadi se inició a propuesta suya

dos artículos referentes al aumento de representación y cito literalmente un representante de las cooperativas de enseñanza y pudo haber incluido en ese momento a los grupos parlamentarios y no lo hizo

a quiénes debían tomar parte en el consejo escolar de euskadi y cada uno de los grupos tuvimos la oportunidad de hacer nuestras propuestas y aportaciones dicho esto y como ya

elkarrekin podemos no concebimos políticas educativas que no cuenten con la participación activa

y en estos momentos disponemos de consejo escolar como órgano superior de participación de los sectores sociales implicados en la programación general de la enseñanza

disposiciones generales y reglamento propuestos por el gobierno vasco sin embargo consideramos que este marco de participación está obsoleto y necesita un cambio profundo y no solo en los artículos mencionados sin embargo lo que no nos explicamos es primero por qué no incorporó esta demanda

por qué lo hace ahora y mediante una proposición no de ley así las cosas

ni en forma y vamos a votar en contra más allá de las consideraciones que podamos hacer en relación a su contenido

señora bengoechea yo tampoco entiendo muchas cosas así es la vida no cuestión de visiones y un aprendizaje continuo de saber perder y saber ganar pero bueno alegres y combativas

están representados muchos actores pero en lo que se refiere a actores políticos estos están representados por medios de eudel lo cual es un poco chocante decía porque educación como tal no es una competencia de los ayuntamientos es una competencia del gobierno vasco controlado por el parlamento vasco bueno pues los representantes políticos están representados por medio de su participación

y añadía que no le parecía correcto porque su grupo había tenido responsabilidades de gobierno en algunas instituciones en el pasado pero que en estos momentos no sucedía en resumen decía que era una injusticia es más dijo literalmente que les habían echado pentsatu nahi izan nuen barrua husteko beharra izango zuela egun hartan

el resto de grupos de la oposición se acordasen tanto de las competencias impropias que decía ahora

muchos y muchos debates muy concretos acabamos apelando a la colaboración de los ayuntamientos vascos y entonces no les parecen a ustedes competencias impropias de las instituciones

bueno hay una cosa que tengo que agradecer a todos los grupos

la importancia que nuestro grupo da al consejo escolar de euskadi porque trajimos la reforma de la ley conseguimos que las cooperativas entraran creo que gracias a nuestra iniciativa

consejo escolar de euskadi más completo más rico y con mayor proyección y como todos ustedes lo han reconocido

han hecho varios de ustedes y por qué han utilizado una proposición no de ley bueno si ustedes leen lo que nosotros

no es que esto se haga ya como si fuera parte de una ley proponemos en la próxima reformulación y no les puedo garantizar

no se nos ocurra otra forma de mejorar el consejo escolar vasco porque vamos ustedes parecen que como ya se hizo va a ser

que según vaya pasando el tiempo nosotros pensemos en otras maneras de enriquecer y de completar semejante consejo

llevo tiempo preguntándome y quiero ponerlo en común con el grupo porque el ivei

porque el ivei es una fuente muy importante para el consejo escolar de euskadi

que da el consejo escolar de euskadi que es

negativos pero este a mí me estremeció particularmente

que en las calificaciones que logran nuestros jóvenes en los centros son siempre superiores

estadísticamente superiores a las que consiguen cuando es el ivei u otro órgano exterior el que la hace

importantísimo algo está pasando cuando los centros califican a los alumnos de forma superior a como lo hace el ivei

dicen que tiene que estar la comunidad educativa la comunidad educativa

yo creo que los grupos políticos e incluso este parlamento también es parte de la comunidad educativa

ya comprendo por qué resulta que las personas que nos dedicamos a la política

no somos parte de la comunidad educativa vasca no nos mezclamos y luego además si proyectamos que no alcanzamos acuerdos cuando los alcanzamos tanto y cuando personalmente nos estimamos pero qué se creen ustedes que el que estemos allí

todo aquello que podamos y para respetarnos pero claro ustedes es que de las personas que nos dedicamos a la política y de este parlamento

aislado que yo desde luego no comparto etxe honetan bai kaleetan ere bai eta consejo de euskadin baita ere

que no están como partidos que están como representantes de los municipios razón de más para que estén los que representan entre otros a toda la comunidad escolar de euskadi que son los miembros de este parlamento a mí eso me parece fundamental

otra cosa apuntada pero no entiendo no me entiendo ni a mí misma

somos miembros de la comunidad educativa en euskadi somos personas que van a buscar el consenso no a montar bronca en general excepto en casos muy esto somos personas que no debemos aislarnos de la sociedad y ya

lo ciframos en una próxima reformulación y ya les digo que no les garantizo que en nuestro afán de mejorar el consejo escolar de euskadi no vayamos a traer más cosas como forma de pnl eso sí para la próxima reformulación

y ya le digo a mí lo del ivei me está dando vueltas en la cabeza quizá si mis compañeros de grupo lo aprueban
pueda traer otra para decir que el ivei también esté ahí eskerrik asko eskerrik asko de bengoechea gauza bat bakarrik barkatu eta bai ubera andrea baita gu ere

zertan behar dituen edo zertan behar ez dituen eraldaketak luego de repente nos ha convertido

a todos y a todas a los setenta y cinco en comunidad educativa hasta ahora yo creía que la comunidad educativa creía que estábamos de acuerdo en lo que era

pero resulta que no yo creía que cuando aquí hablábamos de comunidad educativa hablábamos de los profesionales que trabajan día a día en el ámbito de la educación que hablábamos de la administración educativa en su conjunto

de los expertos y las expertas en materia educativa que hablábamos del alumnado que hablábamos de las familias yo creía que hablábamos de eso

no sé si también somos comunidad sanitaria cuando hablamos

o ferroviaria somos todas las comunidades lo que pasa es que somos los representantes de toda la sociedad vasca cada uno con su peso específico en esta cámara

a toda la ciudadanía eso quiere decir que somos comunidad educativa no quiere decir que tenemos que interactuar

claro que sí tenemos que mantener un contacto y un diálogo permanente con todos aquellos agentes todos aquellos colectivos que forman parte de la comunidad educativa pero desde luego nuestro grupo no se considera comunidad educativa somos todos representantes de la ciudadanía vasca desde luego no somos comunidad educativa eso sí tanto nuestro grupo parlamentario como el gobierno vasco mantienen un contacto permanente con todos

erreparazioa ematean en el caso de las víctimas de la violencia machista se entiende que el fin es la mejora sustancial de las condiciones de vida de las víctimas a partir

y recuperación así mismo se ha de apoyar el proceso de empoderamiento que refuerce su capacidad y autonomía para superar la situación de violencia

en materia de atención a las mujeres que sufren violencia machista en nuestros pueblos y ciudades bajo el impulso coordinado del personal político la intervención en reparación resulta clave para ayudar a la restauración de la vida comunitaria y la reparación social y pública de las víctimas y supervivientes

el parlamento vasco se compromete a actuar para cumplir los compromisos políticos y con ello poder contribuir en la erradicación de todas las formas de violencia machista biktimen